álvaro gotxi garcía jauna arantza fernandez de garayalde ulacia andrea

más veces repetidas y a su vez menos ciertas

año en el que se produjo un incremento de casi un nueve por ciento en el precio del alquiler es un año en el que no existe una especial contracción de la oferta de vivienda en alquiler

viviendas todo un récord histórico por lo tanto serían ustedes

en qué momento se experimenta el efecto del incremento en la oferta en la curva de precios en qué momento tranquilos

porque no hay tal contracción del precio avancemos en el tiempo hasta el día de hoy algunas voces

tendría un efecto positivo en el precio del mercado de alquiler bien pues qué podemos observar pues observamos que un año después un año después el incremento de la oferta y la retracción de la demanda apenas han hecho descender el precio de la vivienda libre en alquiler de hecho en el último trimestre

el precio ha vuelto a crecer decía un buen amigo mío profesor de la universidad de barcelona que los mercados perfectos solo existen en las facultades de economía y tiene razón

ejemplo de ello hace tiempo que dejó de estar sometido exclusivamente a la lógica de la oferta y la demanda para regirse por el principio de la expectativa de beneficio y así dominados por el culto al mercado perdemos generaciones de jóvenes mientras esperamos paciente e indolentemente

si así puede considerarse que yo no la considero me ofende

sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho

a este respecto y el informe este informe de naciones unidas dice así la actual crisis mundial de la vivienda

anterior de este tipo no lo ha causado una disminución de los recursos ni una desaceleración económica sino el crecimiento económico la expansión y la creciente desigualdad la vivienda se ha convertido en un impulsor clave de la creciente desigualdad socioeconómica

y llevar aquellos que no a una situación de más endeudamiento y más pobreza bigarren atala

ondorioez mintzatuko naiz la espiral de incremento del precio

que arroja a miles de personas a los márgenes de nuestra sociedad la vivienda es la dimensión que genera situaciones problemáticas a un mayor porcentaje de nuestra población una personas los más de ochocientos desahucios anuales como consecuencia de procedimientos derivados de la ley de arrendamientos urbanos son si quieren la expresión más extrema y más visible de la problemática asociada al incremento del precio de la vivienda en alquiler estos márgenes estos márgenes en absoluto marginales porque no son minoritarios tienen género al igual que cualquier otro fenómeno de desigualdad que analicemos la dificultad en el acceso a la vivienda se encuentra también feminizada la brecha salarial

las mujeres deben destinar el setenta y tres por ciento de su salario a pagar el alquiler trece puntos más

además esta desigualdad es galopante entre dos mil quince y dos mil dieciocho el número de mujeres inscritas

márgenes con género pero márgenes también con edad de hecho una persona joven debe destinar el setenta por ciento de su sueldo para pagar

poner el foco en la gravísima problemática generada entre la población joven nos lleva a ser conscientes de que el elevado precio del alquiler no solo compromete el derecho a disfrutar de una vivienda digna sino que arrastra consigo otros derechos

erabakitzeko durante el debate de enmiendas a la totalidad del proyecto de presupuesto

se orientan principalmente hacia lo que denominó decrecimiento aspiracional

y tiene razón las aspiraciones de miles de personas sobre todo jóvenes se ahogan dentro de la tóxica burbuja especulativa del mercado de la vivienda en alquiler

urteetan segregación barrio rico

riqueza pobreza desigualdad en palabras del economista francés thomas piketty

algunos tienen que alquilar toda su vida otros reciben rentas durante toda su vida cómo incidir en ella

supondría incidir en una mejor distribución de la renta mediante la transferencia de riqueza de rentistas a inquilinos además además impedir una desproporcionada extracción de la renta permitiría restar atractivo al rentismo inmobiliario y redirigir esa inversión a la economía productiva

en el que debatimos la posibilidad de limitar el precio del alquiler a la vivienda

del dos mil veinte de la relatora especial de las naciones unidas sobre una vivienda digna la vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa ante el coronavirus pocas veces el hogar ha sido más una cuestión de vida

desgranadas las principales consecuencias de la burbuja instalada en el mercado de la vivienda en alquiler es un

las ventajas que presenta la ley propuesta por euskal herria bildu en síntesis la limitación del precio de alquiler es política de vivienda

es política de distribución de la riquezas es política económica es política

es política de inclusión social es política demográfica de juventud y es política urbanística hirugarren atala jaurlaritzaren iritzia gure lege proposamenari buruz el criterio desfavorable del gobierno vasco a la proposición de ley de euskal herria bildu se basa o

ideología de la desigualdad recurriendo al término de piketty y críticas teóricas

inoportuna un término que reservan al parecer para ventilar las iniciativas presentadas por euskal herria bildu nuestra propuesta presupuestaria según el consejero azpiazu era

es según el consejero arriola también inoportuna el adjetivo inoportuno es definido por la rae de la siguiente manera fuera de tiempo o de propósito

creen que está fuera de tiempo que los limitemos creen sinceramente que está fuera de propósito inoportunidad en cambio

como falta de oportunidad como las oportunidades perdidas por miles de personas jóvenes de nuestro país

oportunidades que nunca volverán momentos que se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia jaurlaritzaren iritzian

no es oportuno que el parlamento vasco aborde la regulación del precio de alquiler

así se resume el criterio manifestado por este gobierno sobre nuestra ley estrategia el perro del hortelano que ni come ni deja comer

de que este gobierno sea claro o se sincere sobre sus intenciones no voy a engañar es previsible que dentro de unos minutos la mayoría pnv pse impida que esta ley sea tomada en consideración pero también es previsible que en unos meses

del precio de alquiler una regulación que según se ha adelantado va a dejar en manos de las comunidades autónomas la aplicación

ante esa posibilidad o mejor dicho probabilidad qué hará el gobierno vasco

el veto que impondrá hoy será extensivo a futuras regulaciones se van a sumar a las comunidades autónomas gobernadas por el partido popular serán parte de la contra

tiene que ayudarnos doctor hemos intentado hacer nada y ya no sabemos qué hacer bigarren galdera

argudio bat eta kontrakoa erabiltzea el siguiente argumento esgrimido por el gobierno contra nuestra proposición de ley es una falacia lógica o un falso dilema contrapone el control de rentas al incremento de la oferta pública en alquiler

u otra política como si tales medidas fueran incompatibles pero qué nos enseña la experiencia internacional a este respecto que son medidas complementarias

masiva de viviendas para incrementar el parque público por lo tanto por qué pretende nuestro gobierno que renunciemos a una de estas dos vías de actuación o a una de las vías de actuación por qué quiere impedirnos que aliviemos inmediatamente

contracción de la oferta el último argumento si es que podemos calificarlo así esgrimido por el gobierno es que produciría una contracción de la oferta

antes ya me he referido a como la ley de la oferta y la demanda ha dejado de ser el principio básico que rige el

mercado del alquiler así que no voy a incidir más en ello sí que les volveré a recordar que

décadas de experiencia existe una escasa o nula evidencia sobre la que apoyar esta afirmación a lo sumo a lo sumo

ante una contracción temporal de la oferta un efecto que dicho sea de paso podría achacársele también a la actuación vía incentivo o penalización fiscal que proponen bueno que llevan cuatro años proponiendo en todo caso si algún efecto negativo colateral pudiera desprenderse de la del precio del alquiler solo tendrían que ponderarlo

ponderen comparen vean qué tenemos al otro lado de la balanza derecho a la vivienda derecho a la educación

derecho a la salud cuarto y último apartado que he titulado el basurero de la historia y ahora les explicaré por qué arestian aipatu dudan moduan hau

lehenik katalunian eta hurrengo hilabeteetan ziur asko espainiako erresuman el veto que van a imponer ustedes hoy

de la realidad social pero también os confina de la realidad institucional que

de las políticas públicas del ámbito europeo y del ámbito internacional al comienzo de mi intervención me refería al informe de la relatora especial

al margen de que este informe hace un diagnóstico de la situación que antes he leído este informe también recoge una serie de directrices dirigidas a los estados

la siguiente medida manteniendo un marco regulador del alquiler que preserve la seguridad de tenencia y la vivienda asequible de los inquilinos por ejemplo limitando los precios de los alquileres imponiendo controles o congelando los precios

naciones unidas en el pleno de control celebrado el dieciséis de octubre el consejero de planificación territorial vivienda y transportes remarcaba la sintonía de sus propósitos con un reciente informe del parlamento europeo titulado políticas para asegurar el acceso a la vivienda asequible el problema es que usted señor consejero practicó el serie picking o

puesto que omitió que dicho informe en su punto trece aboga por el establecimiento de medidas de control de los alquileres más recientemente

el parlamento europeo recordaba a los estados miembros

a fin de garantizar el acceso a una vivienda asequible y adecuada para todos significaría el incumplimiento de sus obligaciones en relación con el derecho a la vivienda

desconozcan las recomendaciones internacionales en políticas de acceso a la vivienda es que han decidido ignorarlas por completo

de la vivienda en alquiler cuenta con un apoyo social mayoritario pronto en unos meses por una vía u otra se va aa institucionalizar a pesar de vuestro veto hoy aquí lo único que vais a ganar o lo único que vais a conseguir es que se demore cuántos proyectos de vida condicionareis durante esta absurda demora cuántos

estáis lamentablemente aislados habéis fracasado

vuestra contrariedad allí donde pertenece al basurero de la historia laburbilduz

esta proposición de ley no es nueva sino que la pasada legislatura ya tuvo un criterio contrario por parte de la consideración

del gobierno vasco esta proposición

y que sin embargo es una modificación de la ley de derecho civil vasco cinco barra dos mil quince de veinticinco de junio y por eso

su proposición de ley empieza en el artículo en el título cuarto

de la ley de derecho civil vasco pero no me quiero centrar en el aspecto más técnico de esta proposición de ley lo que quiero decir es que está claro existe una necesidad de vivienda en el país vasco y que la vivienda que la ley de vivienda vasca reconoce el derecho a la misma

como el gobierno vasco se ha dedicado durante años a la venta de viviendas públicas en vez de a la creación de un parque de vivienda pública de alquiler pues nos encontramos en el año dos mil veintiuno con un grave problema de acceso a la vivienda para miles de familias vascas pero se crea la pcv que es la prestación compensatoria de vivienda para quienes tienen reconocido ese derecho

que no me voy a centrar ahora pero la pcv también tiene

y encima estas pcv no terminan de solucionar el problema de acceso a la vivienda de los vascos

sería aumentar como he dicho antes el parque de vivienda pública de alquiler para atender a las necesidades de los ciudadanos vascos pero claro esto no ha entrado

y creemos que es importante incentivar la puesta en el mercado de viviendas deshabitadas y proponer a los órganos competentes en materia fiscal

por las características de los propietarios que tenemos en el país vasco aquí no tenemos grandes tenedores de vivienda sino que quienes tienen una segunda vivienda como norma general suelen ser personas

de años de trabajo para poder pagar esta segunda vivienda por lo tanto no estamos hablando de especuladores sobre las viviendas sino de gente que bueno ha decidido meter

una jubilación mejor o quizás poder entrar en una residencia no sé cada uno tiene

en qué quiere invertir su dinero o sus ahorros que tampoco son

cuando ustedes proponen una ley muy parecida a la ley catalana

en los contratos de arrendamiento de vivienda de la comunidad autónoma de cataluña que está recurrida ante el tribunal constitucional que aún no se ha pronunciado a mí

de ser prudente y de esperar al fallo de este tribunal constitucional

que en otros países en los que se ha limitado o se ha legislado para

pues lo que se ha producido es un paralelismo de la oferta de las viviendas de alquiler un paralelismo que no ha mejorado la situación de las familias que

la vida de los ciudadanos de los países que han hecho este tipo de leyes ha sido aumentar el número de viviendas públicas en régimen de alquiler

gustatuko litzaidake azaltzea zergatik egia da ikusi genuenean que se usaba el derecho civil nos parecía ciertamente un carácter innovador en esta materia pero más allá de la herramienta en cuestión para regular los precios

es ser pioneros también en esto y poder tener la ponencia de ley abierta en euskadi para que ustedes utilizan la excusa para el argumento contrario en cuanto esté aprobada también la regulación estatal poder aplicarla de forma inmediata en euskadi a través de esas enmiendas a una ley que se vería aprobada en los próximos meses en este parlamento

erakundearen txosten ezberdinetan eso es así pero la realidad nos muestra que ha habido en los últimos cuatro años

en el mercado privado del alquiler solo ciento sesenta y cinco si se puede decir solo en materia de desahucios en

el precio el abuso en el precio y el abuso también en los contratos de alquiler y ahora mismo es verdad hay una suspensión de los desahucios hasta el final del estado de alarma pero que tiene tantos mecanismos tantas oztopos jurídicos que juzgados están actuando de forma torticera y se están produciendo por desgracia también desahucios saben perfectamente igual que yo igual que este grupo que bilbao y donostia son dos de las cuatro ciudades más caras del estado español en el mercado de alquiler

en más de ochocientos sesenta y una de las razones principales por las que en euskadi la juventud se independiza cuatro años más tarde que en la media europea es que tiene que dedicar el setenta por ciento del sueldo de sueldos generalmente de miseria al alquiler esto es lo que provoca exclusión y esto es lo que provoca pobreza en euskadi

la tenemos respecto a europa pues no y los argumentos

excusas que da el gobierno en esos informes que normalmente son bastante vagos a la hora de ir en contra de una ley que hace la oposición dicen que no es adecuada y que va con prisas creo que es una poco empírica definición de lo que es

dice que no resuelve igualmente empírico yo creo que alguien hizo así y según

dicen que seguirán haciendo bien nosotros lo apoyaremos las enmiendas de los presupuestos de este año lo hemos hecho en la negociación presupuestaria hicimos también con el gobierno lo hicimos para aumentar las políticas de vivienda pública en euskadi pero al ritmo que vamos y al ritmo que va el gobierno vasco

no será mejor aparte de hacer más y hacerlo mejor y tener más presupuesto regular el mercado privado del alquiler que además artículo ciento veintiocho de la constitución donde se supedita la riqueza del interés general

de aplicarlo por último dicen una de las últimas cosas que dicen que el control de rentas es un tema puntual hay países en los que se lleva haciendo más de veinte años y la última excusa que se va a aprobar una ley de vivienda en el estado español en el congreso efectivamente pero ustedes igual que yo y seguramente mejor que yo saben que va a necesitar de un desarrollo también

de vivienda porque llevamos cuatro meses de retraso en la presentación de esta ley porque hay dos elementos que no se quieren introducir en dicha ley

regulación expresa del mercado de alquiler y una prohibición permanente de los desahucios sin alternativa habitacional y ahí donde estamos peleando también desde elkarrekin podemos izquierda unida pero porque además sabemos y lo ha dicho

que no le parece un instrumento adecuado por tanto qué hacemos caso

o al dictamen del gobierno sobre esta ley que dice que como se va a aprobar

en el congreso de los diputados pues que luego ya vendrá aquí

que realice el gobierno vasco y haciendo enmiendas para que tenga más presupuesto pero a la vez seguiremos peleando por la regulación del mercado especulativo del alquiler privado eskerrik asko

coincidimos plenamente con el criterio desfavorable emitido por el gobierno como no podía ser de otra manera entendemos que no es oportuna en tanto en cuanto en estos momentos se encuentra en tramitación un proyecto de ley a nivel estatal que lo incluye esta misma cuestión

de los alquileres en relación a nuestras competencias no sé si hay veces se entiende o no se quieren entender determinados posicionamientos en cuanto a la emisión de criterio del gobierno en cualquier caso nosotros lo que sí queremos es legal que nos brinde garantías para hacer políticas de vivienda y políticas de alquiler como decía con plenas garantías no es ánimo de este grupo parlamentario trolear a sus compañeros del gobierno de españa

argumentar otros motivos para el voto desfavorable a la toma en consideración ya que a diferencia del ámbito estatal la situación en cuanto a la cuestión que nos ocupa es ciertamente diferente a la que se vive en otras comunidades autónomas en euskadi

tiene un peso sobre el parque de viviendas principales que se encuentra muy por debajo de la media estatal y muy alejado de los ámbitos territoriales que concentran el dinamismo poblacional en el estado euskadi hoy por hoy

como madrid y barcelona y que se expande además por sus áreas metropolitanas en un efecto

en estas zonas se están produciendo concentraciones y movimientos de inversores institucionales privados fondos

de la vivienda ofertada se encuentre en manos de grandes grupos inversores privados ese es precisamente el motivo por el cual el gobierno españa entendía la necesidad de contar con una ley que regulara los precios de alquileres

tenedores de vivienda una circunstancia que hoy por hoy y afortunadamente no se da

en españa a día de hoy en el ochenta y cinco por ciento de los arrendamientos de vivienda el propietario es una persona física pequeño propietario pequeña propietaria ese porcentaje es todavía mayor en el caso concreto de euskadi ya desde la pasada legislatura el gobierno de coalición sustentado por el partido socialista de euskadi

ha orientado la política vasca de vivienda hacia la apuesta por incrementar la oferta pública mediante la movilización de la vivienda deshabitada y por continuar

desincentivar el establecimiento de alquileres por debajo del mercado está claro que las consecuencias derivadas de la pandemia pueden provocar sin duda un aumento de situaciones de riesgo de exclusión que afecten a los arrendatarios para ello

pnv ha adoptado una serie de medidas para la toma de las cuales no es necesaria aprobación de ley ninguna por ejemplo la suspensión

sin alternativa habitacional y la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual

que se suman además a las políticas habituales de este gobierno como pueden ser

además de otros cuantos somos partidarios de aguardar a esa ley estatal

y nos permita aplicar políticas en base a nuestras competencias políticas eficaces a través de herramientas legales que no nos hagan incurrir en el riesgo de caer en ninguna inconstitucionalidad que invalide precisamente hipotética ley que pudiéramos aprobar aquí en esta cámara en estos momentos en dos mil veintiuno va a ser posible implantar políticas de control de rentas de alquiler

a través de la ley estatal de vivienda aplicables en todos los ámbitos territoriales de estado y con acción pública posible no solo de las comunidades autónomas

de los propios municipios que esto sea el mejor complemento a una ley de vivienda y unas políticas de vivienda que nosotros entendemos que son

denuncié por mis nietos por todos los trabajadores y por mí

un desprecio propio de la edad media una falta de empatía brutal

cuende el trabajador de glovo que llevó a esta empresa a los tribunales y gracias

oficializó lo que todos y todas sabíamos los trabajadores de estas plataformas no son como dijo el fundador de esta empresa

trabajadores que gozan de una gran flexibilidad sino lo conocido en el mundo del derecho laboral como falsos autónomos es decir

cuyas cotizaciones son defraudadas y de cuya salud y bienestar nadie se hace responsable quería comenzar por esta pequeña

victoria del movimiento de los trabajadores de reparto del movimiento sindical de nuevo cuño como los riders con derechos porque da cuenta de dos cosas una

que ha traído consigo el llamado capitalismo de plataformas y dos da cuenta también de la necesidad de que la legislación las instituciones y los distintos órganos vinculados al ámbito laboral y fiscal

una mayor capacidad de respuesta ante la diversidad de formas de infraempleo o fraude relacionados con el empleo que han aparecido en los últimos años

es solo un ejemplo de las diversas formas que toma el fraude laboral fraude que atenta contra los derechos de miles de trabajadores y trabajadoras poniendo riesgo

en el ámbito de las haciendas forales y las cotizaciones a la seguridad social por tanto y antes de entrar en harina en defensa de los principales puntos de la proposición no de ley quisiera así introducir algunos elementos más que demuestran la necesidad que desde la determinación política

para terminar con estas prácticas prácticas fraudulentas que durante la pandemia han tomado otra dimensión

se ha visto sacudido como nunca antes como consecuencia de la pandemia desde inicio de la misma han sido trece mil cuatrocientos noventa

situando la tasa de paro por encima del diez por ciento sin embargo este dato oculta las jornadas reducidas y parciales no deseadas las plantillas

que han tenido que seguir trabajando jornadas completas el trabajo

de las condiciones de trabajo produciendo un enorme estrés social a la ciudadanía resulta indispensable impulsar un trabajo interinstitucional entre la inspección de trabajo las haciendas forales y la seguridad social la articulación de intervenciones conjuntas así como la necesidad de introducir el fraude laboral con trascendencia en términos fiscales en los informes anuales tanto en la inspección de trabajo como de la comisión contra el fraude fiscal

impulsados por el ministerio de trabajo y a los que se han tenido que acoger miles de trabajadores y trabajadoras vascas durante todos estos meses han sido una herramienta crucial para amortiguar el impacto económico de la crisis sanitaria de la covid pues bien hecha la ley hecha la trampa desde la aprobación del real decreto han sido treinta mil órdenes de servicio abiertas en relación con los erte en todo el estado de estos

por distintos tipos de fraudes sociales cometidos al socaire de los erte

multas por valor de ocho millónes de euros cifra a la que se suman dos

de cotizaciones recuperadas que los infractores habían cargado al estado de manera fraudulenta en euskadi han sido dos mil cuatro los expedientes iniciados de entre los cuales han finalizado

de euros yendo directamente a los puntos que mencionamos como disposiciones en nuestra proposición no de ley decir

vista la situación actual de nuevos casos de fraude laboral

creemos que esta cámara debe instar al departamento de trabajo y empleo a promover e intensificar las campañas de sensibilización y prevención del fraude laboral incluyendo su dimensión fiscal asimismo creemos que los trabajadores y trabajadoras

amparados por las instituciones y seguros a la hora de denunciar estas prácticas facilitando el uso del buzón contra el fraude laboral

a este respecto creemos que el departamento de trabajo y empleo en particular la inspección de trabajo debería procurar ampliar los convenios de colaboración

para atajar las prácticas de fraude laboral crónicas pero también

nuevas estrategias de fiscalización y control con el objetivo de desmontar nuevas prácticas fraudulentas de carácter sistémico como pueden ser las del capitalismo de plataformas que mencionábamos antes

tampoco estamos promoviendo en este caso nada a lo que no se haya comprometido ya el consejo vasco de inspección de trabajo y seguridad social y es que en este sentido

esta necesidad y en consecuencia acordó impulsar los contactos con las tres diputaciones forales acuerdos que permitan compartir esfuerzos con las haciendas vascas e intercambiar información con el fin de afrontar la lucha contra el fraude desde todas sus vertientes no obstante la realidad desde entonces ha permanecido inalterada a este respecto

de instar firmemente en esta cámara al departamento y a la inspección de trabajo a que ponga en marcha una colaboración real y efectiva con la seguridad social y con las haciendas forales

en esta línea creemos que es necesario además actualizar los sistemas de gestión de información de los que disponen

impulsando la digitalización para poder hacer seguimiento de esta variedad de prácticas y permitiendo así actuar eficazmente contra el fraude fiscal y laboral

particularmente relevante el que todas estas instituciones tengan acceso cruzado en lo referido a expedientes sancionadores laborales y de seguridad social por un lado y con esa información poder impulsar las intervenciones conjuntas y simultáneas entre todas estas administraciones

es el papel que las haciendas forales tienen que jugar en este proceso bajo el punto de vista de elkarrekin podemos izquierda unida la inspección de trabajo del gobierno vasco debería contar con protocolos que incluyan el traslado automático a las haciendas forales de todos los expedientes e informes emitidos con infracciones laborales acaben o no en sanción con el objetivo de detectar los posibles fraudes fiscales asociados a tales

y facilitar su detección por parte de las haciendas en cuarto lugar junto a la colaboración entre los distintos entre los diversos niveles

es preciso fortalecer la colaboración con la administración de justicia planteamos pues la necesidad de que el departamento de trabajo y empleo establezca los protocolos necesarios con el consejo general del poder judicial la fiscalía general del estado y el ministerio de justicia para que comuniquen a la inspección de trabajo a la seguridad social

de posible comisión de infracción o delito contable fiscal o contra la seguridad social que se pongan de manifiesto en el curso de un proceso en la jurisdicción social

de los expedientes de fraude laboral con trascendencia en términos fiscales y que asimismo estos incluyan en los informes anuales

muchas gracias presidenta miembros de la mesa señor lehendakari miembros del gobierno también al señor proponente

bien se presenta ante esta cámara una propuesta que digamos que suma adiciona o pone en relación dos realidades dos realidades que como diré en mi exposición

también es cierto que son dos realidades distintas una es lo relativo al fraude fiscal un concepto que más o menos pues

todas las personas vamos todas las instituciones personas y demás que se dedican a este sector tienen más o menos admitido pues qué entendemos por fraude fiscal

por vías no legales por vías no legales no pagar impuestos o intentar evadirlos etcétera en el caso del fraude laboral

y por tanto hace realidades hace referencia perdón a realidades diversas por fraude laboral se puede entender lo que nos dice el proponente el señor soto efectivamente puede haber situaciones de contratos falsos yo entiendo que efectivamente es fraude laboral pues un contrato falso simulado no pagar la seguridad social a un empleado tuyo también es

entiendo que también es fraude laboral por otra parte pues por parte también de un trabajador

solicitudes o tener a lo mejor un absentismo no justificado que perjudica también

las empresas instituciones cuando falta uno pues el resto también tiene que arrimar el hombro yo entiendo que ahí también hay un componente de lo que podemos entender que es fraude

bien no obstante la propuesta pues incluye dos cuestiones distintas yo pensé que era porque habían presentado ustedes una propuesta específica sobre fraude laboral que luego retiraron y he visto que a lo mejor ahí un poquito el contenido en el punto cinco de la pnl que se refiere un pelín a la anterior pero bueno están

de manera conjunta nosotros evidentemente somos

como ya lo hemos dicho muchas veces de establecer efectivamente dotar a la administración y establecer protocolos entre las administraciones pues para perseguir todo tipo de fraude se ha llamado fraude laboral en todo el sentido

y también el fraude fiscal evidentemente porque no solamente es una cuestión de falta de cumplimiento de la legalidad sino que también es una cuestión de insolidaridad eso es una cosa evidente

la proposición no de ley que nos plantea sin embargo jo no puedo evitar

el fraude laboral solamente lo cometen los empresarios cuando hombre yo creo que en el ejemplo que le he puesto pues

incurrir en situaciones de un cierto fraude digo por clarificar también los términos

que tenemos que perseguirlas y que corresponde a este parlamento controlar al gobierno y además establecer medidas de impulso político

este tipo de comportamientos y sancionarlo en su caso eso está claro por tanto a mí la oportunidad

en cuanto a su contenido pues como le he dicho hay algunos puntos

no me encajaban un poco porque no solamente se entremezclaban ahí algunas cuestiones sino que bueno por eso presentamos nosotros la

una enmienda a la totalidad una enmienda a la totalidad vimos también que los grupos que apoyan al gobierno los nacionalistas vascos y socialistas vascos

presentado otra enmienda a la totalidad quizá más simplificada más sencilla hombre como corresponde

se trata también un poco entiendo desde el parlamento

que desde toda cámara siempre se establecen para con un gobierno pero bueno intenté hacer un acercamiento para llegar quizá a un acuerdo

de su intervención podrán explicar no entiendo muy bien por qué porque la propuesta que yo les hacía esencialmente implicaba

de la propuesta nuestra que ahora la desarrollaré brevemente que es aumentar

las vascas sino también de comunidades sobre todo limítrofes etcétera que me decían bueno es que eso se va a hacer eh si se va a hacer

una resolución del parlamento que es una medida de impulso político en fin

luego se pronunciarán no quiero entrar ahí pero bueno

le solicitaremos si usted lo estima conveniente votar su proposición no de ley por puntos si usted lo acepta nosotros apoyaremos el punto dos y el punto cinco

de su proposición no de ley presentada por su grupo en solitario por elkarrekin podemos izquierda unida luego en cuanto

otro grupo enmendante aunque luego quizá desarrollaré un poco más pues hombre me parece quizá

demasiado digo laxa o sea básicamente la propuesta lo que dice es ya se está haciendo todo

yo creo que aquí efectivamente sí que se le puede exigir al gobierno un mayor compromiso impulso etcétera si ya se está haciendo yo no veo ningún problema en aprobar una pnl es más podría ser un tanto a favor del gobierno oye

parece que según los otros grupos enmendantes va a cumplir perfectamente pues yo creo que es

además respeta perfectamente esa función de control que ejerce el parlamento y ya en cuanto a nuestra propuesta

que al final parece que casi defenderemos nosotros en solitario

ya les anuncio nuestra propuesta lo que pretendía simplemente se sintetiza todo en dos cuestiones reconocer efectivamente que es un problema grave

y proponíamos dos cuestiones proponíamos aumentar y así lo hicimos en trámite presupuestario así lo hicimos presentando una enmienda además aumentando

para aumentar y mejorar la formación de la ertzaintza en tema de persecución de delitos económicos y demás la presentamos fue rechazada como todos ustedes saben

planteamos que se inste al gobierno vasco a incrementar la dotación de medios y la formación que probablemente nos dirá y además está aquí presente el señor consejero

pero me parecía una cosa importante sobre todo mandar un mensaje claro desde este parlamento de que efectivamente hay un compromiso por parte también de la modernización de nuestra policía hacer hincapié en la persecución de este tipo de delitos delitos ilícitos

una propuesta que hacíamos por tanto era esta mejorar la formación de

y la otra consistía en aumentar instar al gobierno y a las instituciones tanto forales como incluso ayuntamientos etcétera

abiertamente no o dándole margen de maniobra a las instituciones para que aumente la colaboración con el resto de administraciones nacionales del estado y regionales sobre todo las limítrofes no solamente no solamente hay acuerdos efectivamente con navarra que es la administración foral más parecida quizá a la nuestra y demás

parece que no ha merecido el apoyo de los grupos mayoritarios que prefieren votar

lógica política pero bueno la verdad es que me interesa mucho escuchar las razones que llevan a los grupos enmendantes que sustentan al gobierno las razones

su enmienda y luego rechazan la que ha presentado el señor sordo y por ejemplo la alternativa que hemos presentado nosotros tengo mucho interés en escucharles

se lo cuento de mil amores yo voy a empezar diciendo algo que es evidente compartimos palabra por palabra y punto por punto una afirmación que es la de la necesaria colaboración interinstitucional si queremos adoptar medidas que sean eficaces en la lucha

no es que precisamente esta conclusión es la que nos hizo los socialistas

de la mesa medidas ya hace unos cuantos añitos si hacemos un mínimo ejercicio de memoria yo creo que cualquiera puede entender

contra el fraude fiscal y contra el fraude laboral no me voy a retrotraer hasta el pleistoceno superior porque tampoco es caso

en algunas de las cuestiones que expresamente se recogen en la iniciativa que plantea podemos

una de sus funciones la elaboración de un plan anual conjunto de lucha contra el fraude fiscal

están aquí desde siempre de hecho son bastante menores de edad

y si podemos hablar de ellos es porque en el año dos mil trece los socialistas pusimos encima de la mesa la necesidad de crear estos órganos a cabo estas actuaciones para contemplar en la lucha contra el fraude fiscal a euskadi como un todo como un país no como tres territorios estancos y aislados entre sí

blanco y lo planteamos como una cuestión irrenunciable para llegar a un acuerdo presupuestario y fiscal con el partido nacionalista vasco que entonces gobernaba en solitario

y lo acordamos y juntos lo pusimos en práctica y sinceramente creo que el tiempo nos ha dado absolutamente la razón y a partir de ahí dimos un paso de gigante un paso que ha permitido avanzar y que sigue permitiendo avanzar precisamente en la necesaria colaboración interinstitucional que tiene que haber

el fraude fiscal y el fraude laboral y efectivamente también creemos los socialistas

pueden ir de la mano fíjese tanto lo creemos tanto lo creemos

mi hoy compañera de bancada socialista maría jesús san josé que entonces era consejera de trabajo y justicia también lo puso encima de la mesa y desde el año dos mil diecisiete que este es un dato muy importante la inspección dependiente del gobierno vasco cuenta

haciendas de la comunidad autónoma y es verdad lo voy a reconocer que al principio la información llegaba con cuentagotas es cierto y se puso encima de la mesa esta cuestión para solucionarla y el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve

en esta misma cámara nos informó de que las diputaciones forales estaban centradas ya en la sistematización del intercambio de datos con la inspección laboral y a nosotros esto nos parece muy importante porque precisamente gracias a estos mecanismos de colaboración

puede derivar también en un análisis de las obligaciones fiscales de esa empresa como ven no hemos estado parados más bien todo lo contrario y en ese sentido

de hecho yo le voy a ser sincero creo que lo que nos plantea su iniciativa no aporta absolutamente nada nuevo a lo que ya se está haciendo y se va a hacer dicho de otra manera

en esto somos más ambiciosos que ustedes y le voy a poner ejemplos concretos en el primer punto hablan de intensificar las campañas de prevención y sensibilización contra el fraude laboral a la potenciación del denominado buzón contra el fraude desde el año dos mil diecisiete el gobierno vasco a través de la inspección de trabajo ha intensificado todas sus campañas contra el fraude laboral en todas sus vertientes y además conocen los resultados gracias a esto hemos podido transformar y ajustar a la legalidad

contratos y también se ha articulado los mecanismos de colaboración para abordar la dimensión fiscal del fraude laboral

ya nos anunció su intención de intensificar aún más estas campañas continuar con el plan especial de inspección contra el fraude en la contratación

al papel importante del buzón contra el fraude laboral lo ven nos están pidiendo lo que ya se está haciendo pero se lo he dicho es que se quedan cortos la vicelehendakari idoia mendia fue bastante más allá y añadió un compromiso para realizar una campaña específica

sumar efectivos a la inspección contemplando tres inspectores más y la creación de cuatro plazas este año diez más para esta legislatura pero lo más importante señor soto

nosotros seguimos concretándolos en hechos y los presupuestos que se están tramitando en esta cámara contienen precisamente y cuantifican todas

estas medidas en el punto dos y en el punto tres

y se centran en permitir la actuación conjunta de la inspección fiscal y laboral

y que precisamente gracias a esos convenios la inspección de trabajo ya traslada a las haciendas forales los datos necesarios de todas las actas de infracciones laborales que se solicitan con el objetivo de detectar fraudes fiscales asociados a dichas infracciones y otro dato más importante esto se hace con independencia

o no lo que ustedes piden y con carácter general

ampliar y mejorar los procesos de intercambio y estamos de acuerdo tan de acuerdo que se recogen en los planes anuales para la actuación de las tres diputaciones forales se hace lo que usted nos pide y finalmente en lo relativo al intercambio de información entre el ámbito judicial ministerio fiscal

pues a mí me ha sorprendido bastante porque lo cierto es que esa relación también existe es fluida

respecto a la inspección laboral cuando en una actuación de inspección laboral un inspector cree que puede dar lugar a la comisión de un delito informa al ministerio fiscal

se establece un procedimiento por el que de oficio puede llegar incluso la inspección laboral a la jurisdicción social eso ya está recogido del ámbito judicial hacia la inspección laboral pues ahí está la ley veintitrés barra dos mil quince

que dice taxativamente los juzgados y tribunales facilitarán a la inspección de trabajo y de oficio a petición de la misma los datos de trascendencia para la función inspectora que se desprendan de las actuaciones en que conozcan y que no resulten afectados

y de otra parte por lo que se refiere a la comunicación del ámbito judicial con las haciendas forales pues otro tanto de la misma yo le doy un dato

se hace referencia precisamente a la ejecución de las sentencias condenatorias por delitos a hacienda pública léalo así como a los nueve informes

al ministerio fiscal en los que se ha apreciado un delito contra la hacienda pública y otros dos informes en los que en el proceso de una investigación se ha visto que podía haber otro delito que no era contra la hacienda pública pero también se pasan al ministerio fiscal yo voy concluyendo señora presidenta como he dicho al principio de mi intervención

y contra el fraude laboral fruto de esas propuestas en los últimos años

con un plan anual conjunto y la implementación de mecanismos que se mejoran año a año

entre las administraciones tributarias así mismo en la pasada legislatura pusimos el foco en el fraude laboral y saben que hubo actuaciones que han conseguido la regularización

contratos y hoy ese compromiso sigue vigente

ha dicho que es un eje prioritario de actuación de su departamento y los presupuestos que se están tramitando en esta cámara son el mejor compromiso porque recogen y cuantifican precisamente todas y cada una de estas actuaciones esto no significa que esté todo hecho evidentemente no

e implementando estos sistemas de lucha contra el fraude fiscal y contra el fraude laboral pero es que ese es el compromiso que hemos adquirido precisamente desde este gobierno

recojamos la necesidad de continuar con este trabajo que como ven ya se está haciendo nada más y muchas gracias

honi lo ha hecho el señor rico un planteamiento argumental

acertado evidentemente que yo diga esto no es una sorpresa para nadie a nadie escapa que el señor rico y yo estamos coordinados en esta cuestión en lo esencial

de esta iniciativa teníamos inicialmente la misma impresión desde el primer momento por ello compartiendo

mi propio análisis quizás desde otro ángulo herramienta de impulso con esta iniciativa iniciativa del señor hernández

soto entiendo señor soto sí se miran ustedes pero

firmada por usted entiendo señor soto me voy a dirigir a usted que quiere impulsar la acción de este gobierno

las dos páginas con mucho detenimiento su justificación hace una descripción y le cito como hoy nos ha recordado con lo cual coincidimos en eso también en lo esencial una descripción del mundo del trabajo que se ha visto

de la pandemia y va dándonos detalles que lo avalan en general puedo estar de acuerdo con su descripción terminada esa parte determina una necesidad la necesidad de coordinación institucional para evitar el fraude laboral y el fraude fiscal

tipo de prácticas de acuerdo de acuerdo además

también de acuerdo y para cubrir esa necesidad para superarla nos plantea una parte dispositiva con cinco puntos nos da sus soluciones a esta cuestión en el primer punto el parlamento vasco insta al departamento de trabajo y justicia del gobierno vasco un inciso

actualícense al departamento de trabajo y empleo en esta legislatura

iniciativas me parece estupendo pero hay que adecuarlas también al momento y es que no es una vez es en todo el texto constantemente en tres de los cinco puntos decía

particularmente informará y animará a trabajadores y a trabajadoras a denunciar este tipo

al terminar de leer estas dos caras me apareció una imagen en forma de recuerdo un problema de física del bachillerato

problema va a usted señor soto por una recta y con las manos adelantadas con intención de impulsar

ese objeto que intenta impulsar es la acción de este gobierno usted va a cinco kilómetros por hora y el objeto que pretende impulsar va a ochenta kilómetros por hora

este es el momento en el que pregunto a la profesora de física que está dictando el problema

y el objeto a cinco y me responde que no me responde que el señor soto pretende impulsar un objeto que va mucho más rápido que él un poco disgustado

impulsa al que va más lento me pongo a hacer los cálculos aunque ya intuyo que el señor soto el señor hernández va a ser arrollado por el objeto va a ser arrollado por la acción de este gobierno esta es la imagen que me evoca su iniciativa aunque tengo que reconocer que ha mejorado respecto a la iniciativa que registró un mes antes a la que también ha hecho referencia el señor gordillo sobre fraude fiscal aquella no sobre fraude laboral y que retiró que retiraron ustedes entiendo que para interponer esta usted se apoyaba solo en el fraude fiscal vamos que iba a dos coma cinco kilómetros por hora no un buen avance

después de esta imagen inicial me gustaría recordar dos ideas mucho más cercanas en el tiempo ambas del pleno de presupuestos de la pasada semana en la que se debatieron las enmiendas

elkarrekin podemos ezker batua presentaron y le cito a la señora berrojalbiz cuestionar que el empleo no es la prioridad de este gobierno es no haberse leído la primera página de berpiztu

pues bien parafraseando a la señora berrojalbiz plantear esta iniciativa señor hernández señor soto es no haberse leído el área de actuación

en concreto el compromiso nueve lucha contra el fraude laboral y refuerzo de la inspección de trabajo plantear esta iniciativa

estratégicas del departamento ni en la de los presupuestos del departamento presentaciones realizadas por la sailburu en noviembre y diciembre pero me extraña me extraña esto porque yo recuerdo que usted señor hernández estaba allí en ambos casos y parecía estar cogiendo notas no sé igual ahora no se las ha pasado al señor soto pero la iniciativa ya estaba planteada por otro lado

se centró en un detalle argumental muy acertado a mi juicio

poniendo encima de la mesa un proyecto de presupuestos con un fuerte incremento en esa cuestión

habiendo ese fuerte incremento pregunta a la que no contestaron por cierto

me molesto la utilización de ese argumento vacío de falta de compromiso este gobierno está haciendo y pretende hacer más y la prueba fehaciente de ello es el impulso que se da

es el impulso que se da a este capítulo en el proyecto de presupuestos

yo sí puedo señor soto señor hernandez ponerle un preciso

hoy esta iniciativa esta iniciativa que nos traen no voy a desarrollar mucho más los detalles para tampoco

aburrirles con el planteamiento de detalles

pero señor soto leyendo su iniciativa el gobierno vasco y las diputaciones forales ya cuentan con los mecanismos de intercambio y coordinación

plantea establecer porque lo que usted plantea es establecerlos establecerlos

de su iniciativa por ello en nuestra enmienda defendemos seguir manteniendo esos convenios de colaboración que ya existen hace mucho tiempo como se ha recordado

que se continúe haciendo seguimiento específico de los expedientes de fraude laboral con el objetivo de poder esclarecer el fraude fiscal que ya se hace

las enmienda a la totalidad de los grupos que soportan al gobierno es como un poco

yo no veo que este tema sea diluido yo veo más diluido quizás

que nos dice establecer también con lo cual la crítica sería la misma pero mecanismos más intensos

determíneme la intensidad más en detalle como ya se ha dicho entre la inspección de trabajo

forales hay convenios de intercambio con doble flujo y todos los detalles que el señor rico ha comentado la comisión de lucha contra el fraude se establecen anualmente los planes y acciones

intercambios automáticos de información entre las administraciones avance en base a las modificaciones en digitalización etcétera etcétera y a todas estas medidas

de revisión comprobación e inspección de las diputaciones forales por todo ello nosotros creemos que debemos seguir manteniendo e impulsando esas acciones y así lo defendemos en nuestro texto y sinceramente señor soto

sus iniciativas ninguna medida que mejore o revolucione esta acción más bien más bien lo único que ustedes han hecho es confirmar el camino que este gobierno y las diputaciones forales llevan mucho tiempo

zerbait berria porque esto no es algo novedoso y desde luego no es algo que pase de vez en cuando y las jóvenes por ejemplo sabemos perfectamente qué supone

para casi todas las jóvenes en un primer momento y los que contratan a personas jóvenes casi lo toman como un modelo de actuar

normal todas esas jóvenes que son contratadas como falsas autónomas en las economías de plataformas en lo que se ha venido a llamarse como uberización de la economía con el único objetivo de pagar salarios miserables y no asumir ninguna obligación en el cumplimiento de los derechos laborales básicos

coste alguno en materia de seguridad social y los impuestos que les corresponden o aquellas becarias que con contratos de formación o contratos de prácticas sin ningún objetivo formativo sino justo lo contrario con el único objetivo de sustituir empleo ordinario pero claro a menor coste qué baratas les salen a algunos las becarias en algunos casos

de contratos temporales de escasa duración y salarios muy muy bajos y claro cómo no hablar de la reforma laboral el mayor fraude de ley convertido justamente en ley eta esango digute gainera

del catedrático ignacio zubiri palabras que expresó aquí mismo en el parlamento vasco

hacía una pregunta que era cuánto recaudan las haciendas vascas en la lucha contra el fraude imposible saberlo porque cada una contabiliza cosas diferentes cuántos inspectores fiscales

que la información sobre el fraude fiscal en las diputaciones a su vez extendía esto al fraude laboral

si se hace mucho en contra del fraude en euskadi lo que sí es cierto es que la sociedad cree que no porque así lo indican las encuestas lo que sí que es evidente es que la realidad les arroya

lo que la realidad hace con los planteamientos que el gobierno vasco aplica en relación con el fraude fiscal y laboral es que la realidad les arroya porque pese a los

son de valorar sí que es cierto que a la vista de lo que la ciudadanía

de la realidad así como la propia representación sindical del cuerpo de funcionarios de estas áreas concretas

que es necesario o son necesarios más medios más coordinación y más interlocución entre los diferentes niveles tanto institucionales como administrativos y si esto es así la ciudadanía lo ve así y también el cuerpo de funcionarios

cómo es posible que nos vanagloriemos y tengamos un discurso tan autocomplaciente en relación con el fraude laboral y fiscal porque es básicamente lo que he interpretado deducido de las palabras de los representantes de los partidos que sostienen al gobierno vasco es verdad que se ha aplicado en este caso

en los informes en relación con el fraude tributario y laboral estamos diez años diez años por detrás de lo que a nivel estatal se realiza en cuanto a los nuevos inspectores que se decía que básicamente ha sido el partido socialista quien ha ido ampliando las plantillas en el acuerdo presupuestario del dos mil veinte ya que hablaba de acuerdos presupuestarios fue precisamente

en la plantilla de inspectores en la rama de la inspección de trabajo sí

dos mil veinte también de cara al dos mil veintiuno hemos hecho la misma apuesta no ha sido aceptada por parte de los partidos que sostienen al gobierno la enmienda presentada por nuestra formación política para aumentar el cuerpo de inspectores así que no sé usted dónde ve que nuestro compromiso en este sentido

al suyo porque más allá de mencionar los logros que a su entender el partido socialista ha aplicado en esta materia que desde luego yo no voy a ser quien se los niegue no entiendo por qué utiliza esa terminología para reprocharnos a nosotros falta de compromiso en ese sentido en relación con el representante del partido

a la votación por puntos mencionarle que nosotros no demonizamos a la empresa

intervención suya se lo he escuchado y la verdad es que no entiendo por qué deduce

tal conclusión nosotros cuando planteamos

el ejercicio del negocio y de la aplicación de libre mercado lo que planteamos es

para que esta se haga en unas condiciones dignas y que desde luego en este caso concreto garanticen los derechos

presidenta bueno me he quedado un poco igual con las

turno de réplica pero bueno entiendo que también lo han planteado así no bueno vamos a ver en cuanto a la pnl presentada por el proponente bueno ya hemos entrado en nuestra posición sí que compartimos

es una entidad que tiene que estar en constante modernización y por eso nosotros vemos la oportunidad en una enmienda en una pnl de este tipo y creo que implícitamente ustedes también porque si no simplemente habrían votado en contra de la pnl en lugar de presentar una alternativa yo lo entiendo todo

entiendo que los grupos del gobierno lo que quieren es facilitarle al gobierno y por tanto

pero hombre en un tema como este pues hombre yo aquí sí que nuestro grupo por lo menos nosotros sí que vamos

y por eso vamos a votar algún punto de la resolución inicial y les adelanto que también vamos a votar porque seguramente nuestra enmienda no saldrá adelante pero aun así y a pesar de que no han querido o

a una negociación de transacción pero sí que vamos a votar a los puntos dos y tres

se queda muy atrás de lo que nosotros pretendemos porque simplemente dice que el gobierno ya está haciendo todo y que nada que siga así que esto está muy bien pero bueno es mejor que nada y por eso entendemos que esto tiene que estar también encima de la mesa y que la administración el gobierno y la administración tienen que estar permanentemente modernizándose dedicando más medios mecanismos más intensos qué mecanismos más intensos me preguntaba el señor aiartza pues hombre

pues hombre es que vamos a ver mientras siga habiendo fraude fiscal es que es que hay que seguir mejorando evidentemente continuar no pero es que ustedes nos dicen no

mejorar mejorar ir a más pues mire planes conjuntos sobre todo con otras administraciones planes conjuntos compartir inteligencia de investigación en estos sectores que aquí son bastante reticentes las administraciones no solo las locales aquí la vasca

algo sí y luego iniciativas conjuntas también en cuestiones de inspecciones y demás

el señor rico no es que somos más ambicioso que el proponente tampoco le voy a hacer yo el debate al proponente pero hombre ambicioso mire su enmienda que son tres parrafitos muy escuetos de que todo va fenomenal hombre el señor soto dice no es que la ha reescrito ha republicado una que tenía la ha reciclado

pero es un poco más detallada por eso hombre ambición ambición

de lo habitual por parte de los grupos del gobierno lo que hacen evidentemente pues es pararle los golpes que le puedan golpes políticos entiendo que puedan venir al gobierno

la enmienda a la totalidad y la inicial en el tema de las campañas dedicar recursos a campañas y tal

nosotros creemos que el mejor destino de los recursos es precisamente a mejorar la estructura los medios materiales y humanos en síntesis y ya con esto voy acabando pues lo que hace la enmienda de los dos grupos del gobierno menos mal que nos ha dicho el señor aiartza que estaban coordinados si no no nos habríamos

que apoyan al gobierno pero bueno oye que está bien a mí no me han convencido mucho sus razones pero bueno entiendo que tienen mayoría y la van a hacer valer y por eso y con esto ya

nosotros en este tema como en otros que creemos de capital importancia para la sociedad mantenemos nuestra mano abierta y además por eso les digo que a pesar de que

nosotros como la suya se vota en última instancia sí que apoyaremos los puntos dos y tres de su enmienda porque aunque no va

un mayor compromiso arrancar un mayor compromiso siempre al gobierno

por lo menos creemos que es mejor que nada y sobre todo que es bueno tener este debate encima de la mesa porque la mejora de la administración es algo en lo que todos tenemos que estar

gracias señora presidenta qué injusto que el turno de la réplica solo tenga cinco minutos que es cuando podemos

en el debate igual alguna vez le tendremos que dar una vuelta a este asunto dicho esto yo es que creo que

enmienda de podemos sí cinco puntos y si usted me ha oído en esos cinco puntos no dice nada es nada nada diferente a lo que se esté haciendo yo cuando estábamos en la oposición los socialistas nunca concebí nuestra actuación

que metíamos si eran de tres páginas de doce puntos o de cuatro y usted

sabe que lo conciso en muchas ocasiones es mucho más virtuoso que lo que se desarrolla en excesivas páginas yo no vengo a defender una enmienda no no se quede con la enmienda que hemos presentado

y es a que se siga trabajando en lo que se está haciendo y esa es la base principal a que se siga mejorando a que sigan desarrollando todas estas cuestiones

no está todo hecho mientras haya elusión fiscal mientras haya fraude fiscal mientras haya fraude laboral

lo que digo es que precisamente lo que nos propone podemos es lo que está haciendo este gobierno y esa es la gran diferencia los de podemos ustedes tenían una iniciativa la legislatura pasada la han reciclado solamente le han cambiado una cosa que es en relación

dos oportunidades para huir de la propaganda y el autobombo una que me ha parecido muy feo

podemos hablar también de las mejoras que se han hecho también desde el gobierno vasco

de las personas afectadas por los erte y otra cosa que me ha parecido más fea aún usted ha perdido la oportunidad

y para qué piden una solicitud de información documentada a este gobierno pidiendo las inspecciones que ha hecho la inspección de euskadi tiene el dato igual que yo

para decir que no se está haciendo hombre y aquí ha perdido una oportunidad de oro

que no que esto es más serio esto es bastante más serio me dice no es que nos acusa de falta de compromiso pues sí sí sí

pero sabe por qué porque es que lo he vivido es que aquí todos tenemos pasado yo vengo de las juntas generales de bizkaia y en la juntas generales de bizkaia yo era el portavoz de fiscalidad de mi partido y todavía tengo los ojos como platos

cuando pactamos el partido nacionalista vasco y el partido socialista con eh bildu introducir en la norma general tributaria de bizkaia una cláusula antielusión el señor jon andoni atutxa lo vivió conmigo

absteniéndose absteniéndose claro a la hora de la verdad cuando toca votar presupuestos en los que se llevan como son estos presupuestos del gobierno vasco que se están tramitando que llevan todas las medidas que usted pide en esta iniciativa podemos mirando para otro lado ya están otros para hacer el trabajo nosotros nos quedamos con el discurso es que eso es muy fácil así es muy fácil hacer política

una iniciativa de las juntas generales de bizkaia de esta época del pasado

mire ve los sellos partido socialista y partido nacionalista vasco

y yo proposición de norma relativa al fraude fiscal punto primero

para que se realicen estudios periódicos de cuantificación del fraude fiscal y de la economía sumergida y se solicita que se pida a la oct que se amplíen las funciones para la inclusión de estos estudios de forma periódica recuerde el punto quinto de su iniciativa de hoy

para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias punto tercero

de controles coordinados con la agencia tributaria estatal

votos a favor podemos no pero cómo no le voy a acusar de que miran para otro lado claro hombre y yo si esa es su actitud

como una herramienta para hacer cosas de verdad nosotros vamos a seguir en eso

eskerrik asko mahaiburu andrea tres ideas no que están unidas que han surgido a mi juicio eh a mi juicio

bien bien sí estamos de acuerdo pero determínelo

hay que determinarlo no hay que escribirlo eso de que vamos a amplificar

con qué plazos no determinación determinación

en el juego de textos de los que hoy estamos hablando yo me había hecho un esquema

a la iniciativa original a la iniciativa del señor hernández escrita por el señor hernández podríamos haber votado a favor podríamos haber votado a favor claro que sí si hubiesemos seguido un criterio de análisis del tipo a a qué nos compromete esto si lo estamos haciendo si se está haciendo lo está haciendo el gobierno está yendo más allá pero debemos votar a favor de eso

una falta de seriedad de rigor creo que nosotros tenemos que dejar constancia del esfuerzo que hace y que quiere seguir haciendo este gobierno

ahí tiene una de las explicaciones determínelo en un texto y estoy seguro que si después de hacer un ejercicio de

o en la formación que sea yo estoy seguro que llegaremos a un acuerdo

no nos puede acusar a nosotros de falta de concreción cuando todos los textos que yo he visto de acuerdo decía el señor soto la realidad les arrolla no la realidad nos arrolla a nosotros la realidad

pues si la realidad nos arrolla yo le diría ustedes están haciendo muy mal su trabajo porque si hay una realidad que está arrollando

de cuestiones de esa función de impulso de cuestiones que deberíamos hacer para mejorar ese tsunami que nos está arrollando o enfrentarnos a ese tsunami que nos está arrollando realmente

los que están siendo arrollados son ustedes como les he dicho en mi ejemplo que no pretendía darle

la realidad les arrolla pues lo que la idea en círculo determine si nosotros estamos encantados

lo quiere unir con otra idea autocomplacencia decía el señor soto también su autocomplacencia bueno la sailburu lo que dijo aquí en la presentación de las líneas

refiriéndose a estos temas y le cito son nuestros grandes agujeros y los queremos taponar o sea el gobierno

de mejora pero determínenlo y pónganlo en sus iniciativas es que hacen ustedes eso será que

partidos o las formaciones los grupos que defendemos al gobierno

en el juego del debate y en el juego de cerrar textos pero los suyos no lo entiendo con lo cual de autocomplacencia nada

aun así aun no habiendo autocomplacencia y reconociendo márgenes de mejora que ojalá nos ayudasen

aun así este gobierno va a ochenta y pretende ir a noventa y ustedes van a cinco eskerrik asko eskerrik asko aiartza

gracias voy a empezar por dar una serie de datos

de datos en los que nos podemos ahogar si no sacamos lo que realmente interesa no estamos aquí para

en todo lo que hacemos existe una necesidad imperiosa de mejora continua en este y todos los trabajos por lo menos así lo veo yo así veo yo la vida

repito empecemos con los datos que sacamos del eustat en dos mil dieciocho las exportaciones supusieron veinticinco millónes cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos catorce

en dos mil diecinueve las exportaciones tuvieron una variación negativa de un cero coma cuatro por ciento en dos mil veinte

bajamos un nueve coma nueve por ciento viene la pandemia y bajamos un veintidós coma nueve por ciento

respecto al mismo periodo acumulado del año anterior y ahora

otros datos del informe mensual de comercio exterior elaborado por el ministerio de industria comercio y turismo por comunidades autónomas es este texto

una mayor bajada en la tasa de variación interanual en sus exportaciones un siete coma ocho por ciento negativo vamos a ver qué pasa en marzo de dos mil veinte comprobamos que con respecto a las demás comunidades

los que más perdemos con un saldo negativo de un nueve coma nueve en marzo aragón fue capaz de crecer un cero coma cuatro por ciento y ahora cómo estamos pues caemos un diecinueve coma siete por ciento extremadura es la única que consigue una tasa positiva de un cuatro coma uno por ciento de las exportaciones cuando otros están creciendo

y cuando la mayoría cae nosotros somos los que más caemos a mí la lógica me dice que no estamos haciendo bien las cosas pero cuando voy a investigar qué es lo que estamos haciendo me dirijo al catálogo de ayudas que tenemos mediante spri y sí sí tenemos ayudas está

se plantean mediante la agencia vasca de internalización

un total de diecinueve millónes un poquito más de diecinueve millónes

tanto dinero no sé cómo no vamos como un tiro

y mira ahora mismo voy a reducir a mínimos la explicación de cómo funciona el tema de la exportación y lo reduzco a mínimos para que se me entienda un señor invierte su capital monta una empresa una fábrica empieza a

a base de materias primas vende a sus vecinos a otros países de la unión europea

aquí entramos a competir con otras empresas de otros países con otros programas de ayudas si existen y a la vista de los datos que les he ofrecido anteriormente nosotros los vascos no deberemos de ser muy competitivos cuando no crecemos al ritmo de los demás

que los demás y señores sota caballo rey

adoptando la premisa de que si no somos los únicos vamos a ser los mejores

que los demás necesitamos ser competitivos y no solo en calidad sino también en precio nosotros qué hemos hecho

no hemos apostado por ser los mejores aunque reconozco que las calidades de las exportaciones vascas son de lo

en un momento en el que todas las economías están de capa caída baja el consumo tenemos que buscar la manera de poner nuestros productos nuestro eusko label

grosera se necesitan varias cosas abaratar costes

manteniendo y mejorando el poder adquisitivo de nuestros trabajadores pues cómo pues ayudando a la contratación para aumentar la producción de las empresas exportadoras y siempre

ustedes los partidos que sustentan al gobierno me proponían una enmienda en la que daban continuidad a los programas ya existentes que a la vista de los datos

puesto que la comunidad autónoma vasca no es capaz de mantener su nivel de exportaciones y cuando crece

nuestros empresarios no acceden a sus programas que parece que están

y cito textualmente uno de los requisitos de todos los programas vigentes todo servicio subvencionable tendrá que ser previamente solicitado a basque trade

chiringuito obligado a paso de paso obligatorio para obtener una subvención un peaje es que las empresas no pueden acceder a la subvención con el asesoramiento de otra empresa externa por esto

análisis exhaustivo sobre la manera de llevar a euskadi a la resiliencia necesitamos muchas empresas exportadoras

sino exportar mucho para traer dinero aquí las empresas no necesitan solo apoyo a la contratación de personal especializado para las exportaciones en prácticas sino

de operarios para la producción y ampliando los programas de inversión

pero que no deben de ser suficientes cuando los resultados no son los que queremos obtener si nuestras empresas exportadoras

esto lo han visto en el norte de europa hace años nosotros tenemos la oportunidad de seguir mejorando creo que debemos de seguir mejorando

va a hacer que todo el mundo aquí viva mejor y

con el firme objetivo de poner sobre la mesa las reivindicaciones de muchas empresas muchos empresarios que se ven un poquito

del mundo competitivo en los mercados internacionales y no solo

del mundo y me gustaría que tuviesen en cuenta

sincera era la de cambiar la situación

internacionalización lo primero que debía haber hecho después de haber presentado esta iniciativa y de conocer que los grupos que sustentamos al gobierno teníamos una enmienda era haber intentado

no hemos tenido noticias de ustedes si ustedes verdaderamente quieren cambiar las cosas me parece a mí que con seis parlamentarios y parlamentarias poco van a poder cambiar y sobre todo si no tienen ningún tipo de voluntad para llegar a un acuerdo con los dos grupos que conformamos la mayoría en esta cámara en cualquier caso lo que no puede hacer este gobierno desde luego

meterse a gestionar a intervenir a las empresas y a decirles qué deben o qué no deben de hacer porque es intervencionismo y no está en el ánimo de este gobierno

acompañar a las empresas destinar recursos económicos para ayudarles aplicar programas que ya están en marcha y otros nuevos para reforzar esos ámbitos poner a su disposición infraestructuras plataformas recursos

lo que no puede hacer es decirles qué deben de hacer qué no deben de hacer y desde luego intervenir o dirigir sus políticas empresariales y efectivamente

creo que es una herramienta fundamental para el desarrollo económico para el desarrollo industrial para el tejido productivo en este país y concretamente el basque trade investment es un servicio

de la empresa y promover como decía los recursos económicos humanos de infraestructuras que requieren nuestras empresas para ser competitivas en el extranjero qué quiere que le diga yo no sé si usted se ha molestado en conocer en saber cuál es el papel cuáles son los programas cuáles son los recursos

ofrecen a las empresas vascas pero desde luego me parece que no es nada desdeñable usted lo ha dicho los recursos económicos que destina el departamento de desarrollo económico a esta cuestión al igual que a otras no es nada desdeñable pero evidentemente

pero desde luego también está en manos de las empresas el ser efectivos en la internacionalización

en el extranjero en cualquier caso por si no lo sabía esta oficina desde luego ofrece múltiples servicios y múltiples ayudas en varios ámbitos y en varias cuestiones por ejemplo en la orientación

en los servicios de consultoría estratégica y operacional en el ámbito de las compras identificando a proveedores haciendo informes comerciales aplicando logística externa y ofreciéndosela a nuestras empresas en la búsqueda de distribuidores de agentes comerciales

en apoyo a reubicaciones y retornos en colaboraciones en identificación de socios comerciales en la búsqueda de

en agendas con potenciales socios en la gobernanza de la cadena de valor

para llegar a acuerdos también con otras instituciones más allá de nuestras fronteras en el programa de visitas a organismos

en bolsas de contratación de subcontratación perdón en oportunidades de negocios sectoriales que se van a concretar ahora y en un futuro

en estos momentos en servicios ad hoc a las empresas para que su posicionamiento mejore en jornadas de conocimiento en otros ámbitos aplicando por ejemplo programas para la promoción de la venta exterior como el programa

compartido con otro grupo de empresas el programa zabaldu de apoyos a las pymes

internacionalización en el programa sakondu de apoyos a las pymes en gastos de promoción para empresas altamente internacionalizadas que quieren profundizar

mercados en el ámbito de las implantaciones exteriores

del más alto nivel organizando agendas personalizadas con potenciales socios locales con programas de visitas a empresas locales y organismos relevantes

financiación para la propia internacionalización como bien ha dicho con unas cantidades económicas que me parece que son nada desdeñables y que desde luego probablemente sean de las más importantes a nivel estatal y en muchos casos también a nivel comparativo con muchas regiones europeas servicio de asesoramiento financiero

en algún debate en esta cámara también hemos puesto aquí a debate lo hemos analizado profusamente con líneas de crédito sin coste financiero

en fin en muchísimos ámbitos en el ámbito de la cooperación no creo que euskadi este evidentemente sobrado de oportunidades porque la situación que estamos viviendo desde luego es una situación tremendamente

el talento de euskadi que tenemos en el exterior pero me ha dado la sensación en su intervención señora larrea que ha banalizado bastante no solo la labor de este gobierno recursos económicos los programas y toda la infraestructura que pone a disposición este gobierno de coalición a las empresas vascas me parece que antes de traer iniciativas a esta cámara se debe analizar con profusión e independientemente de los datos que nos pueda poner encima de la mesa sí le agradecería que en sus discursos desde luego no

con los programas con las ayudas con las políticas de internacionalización de empresas que ponen a disposición de las empresas de los diferentes territorios del estado los gobiernos que ustedes lideran entonces probablemente quizá se daría cuenta que en euskadi no somos solo

todo lo que está en nuestra mano lo ponemos al servicio de nuestras empresas para que euskadi siga teniendo un nombre y desde luego siga teniendo un posicionamiento en el mercado internacional eskerrik asko eskerrik asko

laguntzak bti es una agencia del gobierno vasco

para dar un mejor servicio a las empresas vascas esta agencia ofrece un servicio a la carta para fomentar las exportaciones y la internacionalización de la empresa promover las actividades encaminadas a posicionarse en mercados estratégicos

así como prestar apoyo en los proyectos financiados por organismos multilaterales sus principales líneas de trabajo son siete

la internacionalización segunda apoyar en los procesos de internacionalización y ampliación de mercados tercera

quinta inteligencia competitiva sexta cooperación y séptima el talento

programas que estamos seguros que se pueden y deben ir mejorando y por ello proponemos en nuestra enmienda continuar trabajando con el sector para ir adecuando estos programas a las necesidades de nuestras empresas

lehenengoa sakondu programa para la promoción de la venta exterior dentro de la línea de trabajo de ampliación de mercados

y la rentabilidad de las mismas apoyándolas con iniciativas de inversión productiva en destinos exteriores es decir impulsar la creación y el desarrollo de implantaciones de empresas vascas en el exterior este programa está destinado a microempresas y pymes radicadas o con instalaciones productivas en nuestra comunidad autónoma y abierto también a grandes empresas con límite de apoyos mínimos se tratan de líneas de crédito sin coste financiero tercero

microempresas y grandes empresas que quieran participar en el diseño y desarrollo de proyectos piloto de inversión pública

la convivencia de realizar un proyecto e inversión pública en el extranjero y producir beneficios tangibles

consisten en ayudas a fondo perdido y el activo más importante de nuestras empresas es el capital humano

ez suntsitzea edota berriak sortzea eragingo du si nuestras empresas son competitivas serán rentables viables serán solventes y sostenibles tendrán éxito

resulta difícil posicionarse a favor o en contra en cualquier caso desde nuestro grupo vamos a hacer una valoración en términos generales respecto a la política de internacionalización de empresas que creemos que debería de ponerse en práctica

en este país y bueno luego haré ciertas consideraciones respecto al texto

en primer lugar desde nuestro grupo consideramos que se deben diseñar estas intervenciones que ustedes plantean

existente de las características y condiciones de la cadena de valor en la que se insertan

mercados en los que podrían insertar su producción es decir que dar cantidades económicas

a empresas por tener menos de doscientos cincuenta trabajadores en términos generales nos parece que no es una política muy acertada por otro lado se debe valorar la adecuación de los distintos instrumentos de política pública

es decir si va a generar mayores empleos si los sectores en los que se va a aplicar este tipo de subvenciones

insisto creo que una política de subvención en la que se da dinero simple y llanamente por contar con menos de doscientos cincuenta trabajadores

creemos que la combinación de estos dos elementos deben sintetizarse en planificaciones estratégicas creemos que tanto las subvenciones como toda la política

de este país debe de estar enfocada en planes estratégicos

subvenciones generalistas como le decía desde elkarrekin podemos ezker anitza creemos que las subvenciones además no son la única herramienta creemos que tal vez hubiese sido oportuno abordar alguna otra que consideramos más acertada

competencia del gobierno vasco pero sí existan las sinergias y las ligaciones con el departamento

el desarrollo de las agencias de desarrollo

que ponen en marcha para incentivar el mejoramiento o la mejora mejor dicho del tejido productivo local de nuestro país siempre garantizando

destinados a demostrar la importancia que tienen las exportaciones en este país es cierto que la economía vasca tiene un nivel de exportaciones por encima de la media estatal

pero todos sabemos que en este país cuando se habla de internacionalización

repetido hasta la saciedad en muchas ocasiones por parte del gobierno vasco poco o nada tiene que ver con el apoyo a empresas medianas y pequeñas sí que es cierto obviamente como aquí se ha

medianas y pymes pero creemos que el centro de la acción del gobierno vasco no va estrictamente a la mejora de este tejido productivo sino que se enfoca mucho más en la extracción de nuevos mercados extranjeros o ayudar a empresas

bastante más grandes que empresas con menos de doscientos cincuenta trabajadores

que no se trata de subvencionar a las grandes empresas que son las que tienen más fuerza

básicamente por lo que le he comentado antes porque la estrategia actual de internacionalización del gobierno vasco poco o nada tiene que ver

por ejemplo realizan como decía antes las agencias de desarrollo local creemos que una internalización que se entiende de forma bidireccional es decir

extranjeros empresas transnacionales fondos de inversión etcétera no es adecuada creemos que se habilita todo un mosaico de políticas que desde la diversidad de formatos opera bajo una misma lógica

y fondos de inversión por encima de cualquier otra consideración

para lógicas de salida al exterior y de alfombra roja para la atracción de inversión políticas por otro lado

como corea del sur o japón no lo hacen basándose en la atracción de capital extranjero sino en el desarrollo de tecnologías propias

abierta concepto que figura en los documentos estratégicos del gobierno vasco como el plan de internalización empresarial dos mil diecisiete dos mil veinte del gobierno vasco

promesa autocumplida garantizando una profundización en la

locales y foráneos en nuestro territorio así desde instancias autonómicas se insiste en que esta apuesta por la internalización empresarial bidireccional no tiene alternativa es decir no existe modelo de gobernanza económica que no pase por una competición fratricida entre territorios para traer capital extranjero o ganar posiciones en mercados

abierta y entusiasta situándose a la vanguardia en lo que respecta a la habilitación

una política consistente en que este conozca las capacidades del tejido empresarial local cuente con incentivos para implantarse y constate a su vez el favorable entorno competitivo

con el que cuenta el territorio una política que prácticamente no establece en sentido contrario condiciones significativas en términos normativos para las mayorías sociales sectores estratégicos calidad de empleo arraigo generación de empleo etcétera en este contexto destacan los dispositivos concretos de política pública

de capacidades empresariales como la generación de entornos o ecosistemas competitivos una de las herramientas más recurrentes en materia de fortalecimiento de capacidades empresariales es la fiscalidad se trata de una de las principales vías de conversión del territorio en un destino atractivo

de unas condiciones tributarias cada vez más benévolas se trata de un camino cuya inercia lleva de forma natural a la conversión del territorio en un paraíso fiscal de facto como ya ha ocurrido en varios países de la unión europa de no toparse con algún límite que lo evite

precisamente en un momento en el que la pandemia de la covid ha sacado a la luz la debilidad de las cadenas globales de valor

y la necesidad de relocalizar circuitos económicos una apuesta que en su vertiente industrial está teniendo impactos

acentuando la crisis industrial que se arrastra ya por décadas en toda euskadi la pérdida creciente de centros de decisión arraigados en el territorio gamesa euskaltel etcétera consolidando la tendencia a la tercialización

que contribuyen a la turistificación de nuestros municipios permitiendo el aterrizaje de gigantes trasnacionales no comprometidos con el entorno en el que operan y responsables de la precarización acelerada de las condiciones laborales a nivel global

como ejemplifica la instalación de la planta de amazon en oiartzun mermando en definitiva las capacidades de intervención público comunitaria en sectores estratégicos de la economía en definitiva

larrea no podemos apoyar su iniciativa básicamente porque consideramos que es generalista que no plantea la necesidad de generar planes estratégicos

que articulen focos de producción

en euskadi sino que siguen en la lógica de la internacionalización a expensas de la pérdida de los centros de decisión en euskadi que es básicamente donde se centra la política industrial en estos momentos del gobierno vasco eskerrik asko

a este parlamento porque veo que hay necesidad de hablar de la internacionalización

quiero he apuntado varias cosas no he banalizado en ningún momento los programas

son más de diecinueve millónes de euros más el dinero que

aquí este tema para que se entienda que hay una incomodidad por parte de muchas empresas que quieren ser competitivas

en los mercados internacionales y que encuentran dificultades

porque he oído que la marca españa lastra pues mire señor no lastra no lastra son sus prejuicios

nosotros como vascos tenemos nuestro nombre en el mercado internacional en el mercado internacional saben quién es vasco saben qué empresa es vasca y tenemos nuestro renombre y españa tiene el suyo

los prejuicios de ustedes españa no solo

empresas públicas de desarrollo mire a mí me sorprendió que el veintidós de diciembre se creara la empresa pública basque trade e investimento do brasil supongo que para explorar el mercado

pero yo no creo y de verdad estos son posturas políticas no creo que nosotros tengamos que crear empresas públicas para ver cuál es el mercado en otros países creo que esa es la labor de las empresas ellas ya saben perfectamente cuáles son los mercados porque

internacionalizando sus productos son muy conscientes de que tienen un problema de competitividad

tienen un problema con los precios de los productos entonces claro

de opiniones políticas y creo que habría que hablar con el sector y preguntarles a ellos qué es lo que necesitan más que lo que nosotros creemos que ellos tienen que hacer se me ha acusado de querer intervenir

ni nosotros nuestro grupo seamos sospechosos de querer meternos en las

totalmente lo contrario sin embargo es importante

estamos haciendo cosas muchas más cosas de las que hacen en otros sitios sin embargo los resultados obtenidos no son los que deberíamos de obtener

que el balance positivo pero tenemos que ser mejores es simplemente una necesidad de mejora continua una necesidad de sacar lo mejor de nosotros yo sé que los vascos

un poquito de no sé un empujoncito y no sé hasta qué punto siguiendo con la misma línea de lo que se está haciendo ahora yo también he citado el programa en el que se subvenciona a las jóvenes con un nivel alto de inglés

sino que yo creo que falta un puntito más que no estamos abordando y que las empresas es una gran demanda del sector

ofender ni banalizar ni no simplemente quería sacar el debate quería que

y de verdad pues cuando si habrá momento de volver a traer este tema y analizarlo más en profundidad para saber cuáles son las necesidades hablar con el sector y sacar todos adelante algo que sea mejor para todos para todos

eskerrik asko mahaiburu andrea yo señora larrea le agradezco mucho su buena intención y

buenistas pero en este caso creo que no ha aportado absolutamente nada al debate más que el criticar por criticar y el poner de manifiesto que de alguna manera usted desconocía muchas de las cuestiones muchos de los programas y de las políticas que hace este gobierno al respecto de la internacionalización en cualquier caso lo que sí me gustaría es que de alguna manera en las próximas iniciativas nos pongan encima de la mesa nuevas políticas

para poderlas debatir e intentar mejorar si fuera posible más allá de análisis vano que usted ha realizado al señor soto bien está muy bien también que conozcamos su opinión su valoración sobre las políticas de internalización de este gobierno pero mire yo sí tengo especial curiosidad en saber cuáles son

me gustaría saberlo me gustaría que vinieran aquí a hacer propuestas concretas que hicieran también iniciativas al respecto de esta cuestión para poderlas mejorar y no sé si comparte las políticas activas en esta cuestión que lleva acabo el gobierno de españa al que ustedes pertenecen y que también

o si tienen un criterio propio divergente de sus compañeros en el gobierno de españa que también sería interesante saberlo si van en consonancia con esas políticas

que se aleja de lo que suele ser la colaboración entre instituciones en esta cuestión

si las considera mejorables las políticas que hace este gobierno lo que le decía traigan ustedes las suyas tendremos oportunidad de debatirlas y de valorarlas al señor iriarte en doble ración de prejuicios en fin yo creo que el análisis que ha hecho ha sido de trazo grueso no lo siguiente

ese sol y olé que a ustedes tanto les gusta acudir cuando tienen ustedes vacaciones y que aquí se dedican a criticar pero después en agosto pierden ustedes el culo con perdón por ir al sur a disfrutar de su periodo vacacional el mismo que traía usted aquí decía usted que la marca españa es un lastre en fin de lastre

lastran las actitudes lastra el no por el no

lastra el sectarismo cuando quiera podemos hablar de todos los lastres que hemos tenido en euskadi

podemos hablar cuando ustedes quieran pero en fin como decía de lastres sabemos más que

yo les invito a que hagan propuestas para intentar mejorar las políticas les invito a que de alguna manera si ustedes ven margen de mejora en los programas en las ayudas en las cuestiones relativas a esta cuestión

que las hagan que las debatamos abiertamente pero que las debatamos con seriedad sin aplicar prejuicios sin intentar ridiculizar y desde luego con un criterio serio para intentar seguir ayudando a nuestras empresas y no para intentar perjudicar marcas que en este caso a lo que se dedican con sus políticas es intentar ayudar a las empresas no solo

de reactivación económica recogida en berpiztu consta de seis políticas y veintisiete líneas de actuación la cuarta de esas políticas

creativas y la internacionalización esta política cuenta con una inversión presupuestaria de mil ciento sesenta y cuatro millónes de euros que se desarrollarán en tres líneas de actuación la primera desarrollo industrial basque

la segunda reducción de coste financiero a empresas y la tercera plan de internacionalización empresarial

donde se propone uno reforzar de servicios de apoyo internacionalización

tercero proyectos piloto de inversión pública en el exterior cuarto desarrollo y captación de talento y quinto impulso de fusiones y adquisiciones internacionales eta hara

aurrekontuetan programas a las ayudas internacionales para pymes

jarraituz eta horregatik entzun ditut hemen podemosi la palabra apoyo a las empresas pequeñas y medianas empresas eh bilduri

no tengo mucho más que decir aparte de lo mencionado en mi primera intervención porque bueno pues no es que haya enriquecido mucho más la proponente en su turno de réplica la propuesta así que en ese sentido decirle

la propuesta respecto a cuáles son nuestros criterios en relación con la política de internacionalización de empresas bueno en primer lugar decir que

que en base a determinados proyectos concretos pensemos que justificamos la política global de desarrollo económico del gobierno vasco es verdad que hay ciertas partidas económicas en el presupuesto ligadas al desarrollo y a la promoción de la internacionalización de empresas pero en cómputos generales abordando la estrategia global del gobierno vasco en relación con la internacionalización de empresas

los últimos tiempos noticia permanente en los periódicos

de capital extranjero lo cual implica en más de una ocasión la pérdida de centros de decisión en el territorio cuando se dice que no queremos o no debemos intervenir en empresas nosotros consideramos que

en muchas ayudas que se plantean por parte del gobierno vasco que tienen que estar condicionadas eso no es intervenir y ese es un planteamiento que nosotros hemos defendido en más de una ocasión que cuando una empresa reciba

del gobierno vasco ya sea mediante líneas directas de subvención o mediante avales estas estén condicionadas al mantenimiento del empleo al mantenimiento de la producción en el territorio en definitiva a que el centro de decisión se mantenga en el territorio

el suyo porque el suyo sí que no sé cuál es más allá de sumarse a las políticas que el pnv decida hacer en esta materia en este país desde hace décadas y en relación

con qué nos une o en qué nos unen nuestras políticas en relación con el gobierno de coalición de españa pues nos une el acuerdo de gobierno de coalición ese que a veces les cuesta tanto cumplir a ustedes

en relación con el acuerdo del gobierno de coalición el programa pactado

insisto ese que tanto les cuesta a veces cumplir por otro lado también consideramos que en relación con la internacionalización de empresas y le decía que antes

que más incentivan y más promocionan la internacionalización y más

en ella son quienes promocionan el desarrollo de los centros de decisión en el propio territorio corea del sur y japón y eso se liga a la innovación y al desarrollo pero liderándolo desde el sector

público no con la permanente retahíla que el gobierno vasco practica que es la colaboración público privada siempre liderando

el sector privado y así además me lo verbalizó la consejera en esa comisión que usted ha mencionado que el sector público no puede ni debe liderar el desarrollo de innovación en este país sino que necesariamente tiene que ser el sector privado la iniciativa espero que ese no sea el modelo del partido socialista desde luego yo

el del gobierno de españa también hay fórmulas de participación en capital de empresas en situación de riesgo

público en empresas privadas que están en dificultades también ese es nuestro modelo espero que también sea el del partido socialista pero

y desde luego en base a lo que estoy diciendo difícilmente podemos apoyar también la enmienda a la totalidad planteada por los partidos que sostienen al gobierno porque le reitero no estamos de acuerdo con el margo global de actuación del departamento de desarrollo económico

como con muchos otros aspectos eskerrik asko eskerrik asko soto jauna

en primer lugar quiero agradecer al grupo popular ciudadanos el acuerdo al que hemos llegado en nuestra enmienda transaccional dicho esto

los dos trabajadores que fallecieron hace un año bajo toneladas de residuos en el vertedero de zaldibar

lo mucho que sufrieron durante los largos meses transcurridos

no quiero ni imaginar lo que aún sienten la mujer sus hijos toda la familia y los seres queridos de joaquín pasado mañana se cumple

desde vox tenemos que denunciar por solidaridad con las familias por la defensa de los trabajadores y por el incumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales

desde el primer momento quedó en evidencia que la tarea iba a ser extremadamente complicada que el reto era enorme que las urgencias eran máximas y desde el primer momento quedó en evidencia que el gobierno del señor urkullu no iba a poner todas las medidas necesarias

el gobierno central ofreció al gobierno vasco la participación de la unidad militar de emergencia para ocuparse de las tareas de desescombro y rescate y su ayuda fue rechazada

porque a su parecer la clave no era sumar recursos si no iban a sumar esfuerzos

señor urkullu por diferentes razones tendría que haber aceptado la participación

porque son profesionales preparados con recursos y con experiencia la unidad militar cuenta con un gran reconocimiento en todo el territorio nacional

una unidad de emergencia preparada para ayudar a todos los españoles incluidos los vascos y yo le pregunto por qué insistía en que no venían a sumar

así de triste y así de sencillo pusieron sus deseos nacionalistas por encima de sus trabajadores de las familias y su desesperación es indecente abandonar a dos vascos enterrados en la basura durante casi un año por ansias nacionalistas

porque esta no ha sido la única vez rechazaron su apoyo en los primeros meses de la pandemia cuando los militares contribuían a la desinfección de residencias de mayores se acuerda

más crítico cuando el covid se cebaba con nuestros mayores que repito era el sector más débil ante la pandemia

a pesar de no tener efectivos suficientes en esas trágicas semanas decidió que la presencia del ejército en euskadi fuese solo testimonial todos sabemos que el gobierno vasco rechaza la ayuda de fuerzas armadas españolas por una cuestión ideológica y nacionalista

el hecho de que las fuerzas armadas sean españolas es mucho más importante que sus conocimientos su equipamiento su disposición su experiencia y su buen hacer en tareas como las que aquí se plantean ustedes van de la mano con bildu y pesa más su ideología que la seguridad de los vascos

pero así es crean que nos gustaría manifestar lo contrario

de todas las personas atrapadas lo que les preocupó y lo que resaltaron en los medios de comunicación fue el rescate de unos expresos de eta

la policía foral no consideró prioritario ese rescate por lo cual los expresos de eta llamaron a la guardia civil curioso este hecho verdad el odio se olvida cuando te sientes en peligro aquellos que en el pasado habrían atentado sin dudarlo contra los agentes de la guardia civil los recibieron casi con honores

enfermizo y eso mismo es lo que ha de primar ante una emergencia real hay que contar con quienes más saben hablen euskera o no lo hablen sean de aquí o sean de allá españoles vascos rumanos

desde vox condenamos su tremenda irresponsabilidad porque ha puesto en peligro una operación tan delicada y necesaria como el rescate de los restos mortales de joaquín beltrán

por una razón tan peregrina como que la ume no viene

si es capaz de esto diga claro a los vascos que la ideología está por encima de la seguridad a día de hoy continúan las tareas de búsqueda de los restos de joaquín beltrán

que la búsqueda de su compañero estaba próxima y desde aquel dieciséis de agosto seis meses medio año de enorme frustración para sus allegados qué opina de la gestión de la búsqueda no hay nada nuevo que aportar nada que mejorar

sepultadas esta proposición no de ley perdería sentido pero por desgracia esa no es la realidad sino todo lo contrario y eso es algo que nadie puede negar de ahí que ahora insistamos en la necesidad de que el gobierno vasco pida ayuda a quien pueda prestársela aunque solo sea por razones humanitarias para llevar a quienes llevan ya doce meses esperando ahí tiene

así una unidad que así misma se define como una de las herramientas de la acción del estado con un inequívoco espíritu de complementar los servicios de emergencia de otras administraciones principalmente las comunidades y ciudades autónomas

no reniegue de ellas por ser una unidad del ejército por tratarse del ejército español voy concluyendo no sin antes celebrar la coincidencia de criterio con el grupo popular ciudadanos lo que nos ha permitido acordar una enmienda transacional para insistir en la necesidad de que se recurra ahora a los servicios de la ume

situación de emergencia como ya se ha demostrado en repetidas ocasiones para sorpresa de propios y extraños somos las únicas fuerzas políticas que defendemos en esta cámara la nación a la que pertenecemos y sus instituciones no es este el caso del partido socialista fiel escudero del pnv cuando se toman este tipo de decisiones a la ciudadanía hay que jugarle al mismo juego aquí y en el resto de españa me imagino a la señoras robles retorciéndose allí donde esté

rechaza la ayuda de cualquier unidad del ejército en el país vasco sabiendo que es para reforzar un perfil nacionalista que no debería ser el suyo

de su evidente desconocimiento de la tipificación de los residuos que durante años

de su responsabilidad en lo sucedido de las consecuencias

que hoy un año después sigue esperando los restos de sus seres queridos para poderse despedir para iniciar su propia remontada

y de mucho dolor eskerrik asko eskerrik asko martínez andrea

gracias presidenta nosotros aquí hoy queremos hacer un reconocimiento a la inestimable labor de la ume creemos de vital importancia que esta

esta unidad en toda españa tenemos una de las mejores unidades de emergencia militar de todo el mundo y como vascos tenemos el derecho de pedir su ayuda en caso de emergencia es más durante el primer confinamiento aplaudimos a esta unidad cuando vino a realizar por ejemplo

porque cuando no hay recursos suficientes para atender una emergencia tenemos la obligación moral para proteger y salvaguardar a nuestros ciudadanos de hacer uso de la ume

no es un arma política para llamarles a su antojo al antojo de unos partidos políticos o para no llamarles para el antojo de otros la política debe quedar fuera

hablamos de emergencias y las emergencias son emergencias independientemente del color del gobierno que nos gobierne las emergencias

viene a salvar vidas señorías así que deberían

porque pensar en las necesidades de los ciudadanos en un momento de emergencia es vital nosotros creemos que la ume tiene que acudir las veces que sean necesarias para ayudar en caso de emergencia es más

aquí hoy ustedes hablan de la necesidad de llamar

para que rescate el cuerpo de joaquín beltrán y mire en su día nosotros pedimos que en los primeros días era necesaria que viniera la ume a rescatar a estos dos trabajadores porque

no sé nos pueden llegar a quedar la duda de si hubiese intervenido la ume o si hubiese ayudado o hubiese venido quizás hubieran podido yo qué sé ser rescatados con vida o no eh o no seguramente

pero queda la duda queda la duda o sea si ustedes no han utilizado todas las armas que tenían en su poder puede llegar a quedar la duda a mí no vale pero sus familias sufren y siguen sufriendo y van a sufrir toda su vida hagamos un uso sensato

hemos llegado a un acuerdo con los proponentes y les voy a leer la transacción vale el parlamento vasco queremos que inste al gobierno vasco a solicitar del gobierno de españa en todas aquellas situaciones de emergencia en las que sea necesario

que de esta forma la ciudadanía vasca disponga de los mismos medios en estas situaciones que el resto de ciudadanos españoles

como en el caso de la catástrofe del vertedero de zaldívar tenemos que tener la certeza de que

todos los medios existentes para atendernos en caso de emergencia de verdad ningún ciudadano vasco puede tener la duda que no se hizo

para ayudar en emergencia en el centro de todo este debate están las vidas de las personas y de verdad que no me imagino a nadie

rechazando la ayuda

porque los efectivos de la ume van a venir a rescatarnos a protegernos independientemente del color de nuestras ideas tengámoslo

zurea da hitza mikrofonoa itzalita hitz egin du o está a punto de cumplirse bueno simplemente saludar al lehendakari a la vicelehendakari quería comenzar
está a punto de cumplirse un año del accidente de zaldibar quisiera comenzar mi intervención uniéndome a las numerosas manifestaciones de apoyo a la familia

manifestaciones que se han venido realizando por los diferentes grupos parlamentarios en las numerosas ocasiones en las que se ha tenido oportunidad de tratar este tema aquí nuestro dolor que acompaña al de la familia el anhelo

es el común denominador de todos y todas las que componemos este parlamento

sí es verdad que me llama la atención sobre todo viniendo del grupo mixto tan aficionado a veces a recomendarnos lecturas de historias a los demás el hecho de que en esta cuestión haya saltado tan de soslayo la cuestión de la historia del contexto histórico

y merece la pena ser contada también esta historia es importante por ejemplo se les ha olvidado decir que la ume fue creada en el dos mil cinco por impulso del grupo socialista

por ejemplo se le ha olvidado decir que la unidad militar de emergencia fue creada con el voto en contra de la derecha

se le ha olvidado decir que mientras la derecha votaba en contra como he dicho contaba con la abstención del partido nacionalista vasco como ve por tanto

y afortunadamente también tiene su futuro efectivamente la unidad militar de emergencias creada insisto por un gobierno socialista

lustros los socialistas vascos no podemos más que manifestar nuestro orgullo y reconocimiento a la labor que vienen realizando desde su creación su labor

la gestión de la crisis sanitaria o la gestión de las graves nevadas que hemos sufrido hace apenas un mes acreditan sobradamente su profesionalidad y compromiso con nuestro país

pero sigamos ahondando en la cuestión he mirado y rebuscado en la propuesta y también en las intervenciones que he escuchado atentamente

he echado de menos algún tipo de referencia al marco histórico al contexto histórico que nos hubiera permitido comprender mejor cómo por qué y para qué se creó aquella unidad

ningún tipo de referencia al marco competencial porque una vez más

que la gestión de las emergencias y la protección civil es competencia de las comunidades autónomas así que es al gobierno vasco a quien le compete la gestión de las situaciones de emergencias

y efectivamente eso es lo que ha realizado el gobierno vasco desde el minuto cero liderar y coordinar las labores de emergencia

y a ello se ha dedicado mire señora martínez

antes de presentar propuestas extemporáneas y totalmente inadecuadas a la realidad de la situación es fundamental conocer las características de un deslizamiento tan complejo como el ocurrido en zaldibar

es preciso saber que estamos hablando de un deslizamiento de prácticamente un millón de metros cúbicos de residuos un reto realmente complejo al que se han tenido que enfrentar un equipo multidisciplinar compuesto por los mejores expertos y expertas

en un gran número de disciplinas la inestabilidad del deslizamiento los incendios de gases los lixiviados el control de escorrentías

el velar por la seguridad y la salud de las personas que allí se encuentran trabajando

a los que se han tenido que enfrentar y todavía hoy se enfrentan con un objetivo prioritario compartido por todos y cada uno de ellos y de ellas el rescatar lo antes pero lo más seguramente posible

entendemos por tanto no faltar al respeto a todas las personas que se encuentran trabajando en una de las misiones más difíciles que seguramente se van a tener que enfrentar en su vida profesional el ritmo no lo marca el número de manos concentradas en el trabajo de rescate los ritmos

no serían en nada diferentes a los actuales por mucha presencia que hubiera en zaldibar de la unidad militar de emergencias desafortunadamente

cada nuevo reto que se plantea necesita un análisis y planificación sereno

pero que tampoco ponga en riesgo la seguridad medioambiental y la salud de la población residente en las inmediaciones y así es efectivamente cómo se está realizando

y los socialistas estamos completamente convencidos eso se lo aseguro de que en el pensamiento y motivación de todas y cada una de las personas que se encuentran allí trabajando la principal de sus prioridades es la de encontrar joaquín y darle el descanso que tanto él como su familia se merece

no distraigamos su esfuerzo con ruido político estéril y absolutamente innecesario nada más muchas gracias eskerrik asko alonso jauna erantzunen

del gobierno vasco y su responsabilidad en el caso de zaldibar

de toda la historia de la ume y lo debatimos por mí no hay ningún problema además le recuerdo que vox no votó en contra

es cierto que la competencia es del gobierno vasco pero no es

dicho esto la prueba de que las cosas se pueden hacer mucho mejor de lo que se han hecho está ahí es evidente

los restos de joaquín beltrán siguen sepultados en algún lugar del vertedero creo que eso es así y nadie lo puede negar esos dramáticos resultados qué muestran muestran a las claras que aquello que se ha hecho desde el gobierno vasco es francamente mejorable creo que también estará usted de acuerdo en eso y no solo lo digo yo le recuerdo una afirmación del hermano de beltrán recogida hace escasos días en un medio de comunicación digital

estamos muy desencantados con el gobierno vasco creo que hay medios y modos de hacer las cosas mejor de los que están haciendo y añade

todo ha sido extraño creo que se están tapando muchas cosas no lo digo yo

es más estoy segura de que ustedes mismos quienes defienden la gestión realizada por este ejecutivo saben que las cosas se podían haber hecho de otra forma y mucho mejor no puedo ni pensar que estén satisfechos con su actuación con los resultados

en estos duros meses que estamos viviendo los partidos del gobierno y algunos de la oposición han demostrado que les preocupa más el autogobierno que la gestión de la crisis sanitaria por ejemplo enfrentar los problemas a la vasca desde euskadi cuando salen mal la excusa es fácil la excusa es que el problema y la culpa es de madrid si no lo hacen mejor es por las limitaciones que pone españa lo estamos viendo y sufriendo ahora con la campaña de vacunación balones fuera y brindis al sol gestión a la vasca que es la mejor gestión posible pero la realidad es bien distinta

dispone repito de profesionales y de tecnología de primer nivel como usted muy bien sabe seguro que además muy útil en este tipo de situaciones seguro es su responsabilidad

antes a ella y solo suya y confiemos en que más pronto que tarde conozcamos otras responsabilidades algunas de ellas penales en la gestión del vertedero en los servicios públicos de vigilancia medioambiental en la gestión que de este tipo de escombreras y de este dramático suceso ha hecho el gobierno vasco y termino con el deseo sincero de que ustedes localicen cuanto antes los restos mortales de joaquín beltrán

pueda despedirse de él para que puedan enfrentar su particular duelo merece intensificar los esfuerzos para que así sea

buenos días señora presidenta buenos días a todas y todos kazetaritza ona zer den azaltzeko esaten da

gracias señora presidenta señor lehendakari miembros del gobierno

una proposición no de ley relativa a la forma en la que

del consejo de administración en este caso del ente público e i te be no sobre la historia de esta enmienda

primero se presentó una inicialmente para para ver de qué manera se

director luego se fue retirando porque claro ya había habido un nombramiento luego se planteó otra para el diseño del concurso público y finalmente se presente una tercera para también los puestos de designación y demás no y de responsabilidad quiero decir que bueno se ve que era un tema

selección de los cargos públicos particularmente del ente público

los plazos y efectuando los nombramientos la enmienda la pnl la proposición no de ley leída en abstracto

en el texto que se plantea podemos entender que puede ir en la buena dirección en el sentido

del personal a través de un procedimiento abierto a través de un procedimiento abierto a un concurso público y yo le añadiría porque es un poco escueta por eso la hemos desarrollado nosotros en nuestra enmienda muchísimo más

la verdad es que lo que hay que reflexionar un poco es la situación en la que estamos y sobre todo qué televisión pública qué ente público queremos qué ente público queremos

de un debate sereno con tiempo y sobre todo para profundizar en ver cuál es el modelo de radiotelevisión pública que nosotros queremos

hay que plantearlo probablemente a nadie en este hemiciclo se le ocurriría

en cambio una radiotelevisión pública parece que sí parece que sí por qué cuál es la razón

yo creo que en esta cámara también hay que concretar nosotros entendemos que sea cual sea finalmente el sistema lo que hay que tener claro es que una radiotelevisión pública y un medio de comunicación pública financiado con dinero público vuelvo a insistir y sobre todo en el fondo cuyos miembros acaba designando el grupo dominante y además en este caso el gobierno pues tiene que tener una triple tarea

de la carta de la bbc tres cosas informar de manera independiente

y luego contribuir a que las personas puedan formarse una opinión crítica para ello es muy importante la cuestión del pluralismo esa es

el modelo que sin duda desarrollaremos nosotros posteriormente a través de alguna otra iniciativa de lo que entendemos que debe ser la radio televisión pública lo que pasa es que claro debajo de todo esto también hay una cuestión política importante

vamos a ver viendo la programación también de la radio televisión pública pues hombre ya lo he dicho aquí en este hemiciclo alguna vez un poco representando la situación parece que hemos pasado del telebatzoki

una televisión y unos medios de comunicación financiados con dinero público que sean independientes

y ahí puedo coincidir en el sentido de que es necesario para esto que el sistema de designación sobre todo de la cúpula que gobierne

pues se haga con una serie de criterios tiene razón la proponente en el sentido de que con la legislación actual y con la regulación actual

y alguna cuestión en materia de proposición pero también es verdad que nosotros vamos más allá y además nosotros proponemos cambiar muchas cosas y entre ellas lo iremos diciendo a través de sucesivas iniciativas

radical de lo que sería la radio televisión pública porque

siempre es una tentación para cualquier grupo de poder y aquí esto hay que decirlo claramente en la etb lo que ha pasado es que hay una guerra soterrada entre partidarios de una bancada y partidarios de la otra bancada

es verdad que hay una bancada que se les ha adelantado no se les ha adelantado en el estado de gobierno en el estado de administración

a controlar más ese tipo de designaciones pero hombre viendo los programas y viendo sobre todo

ciertas emisiones a nadie se le escapa que el sentir yo creo que hay un claro sesgo a favor de lo que defiende una determinada ideología vamos no hace falta ser un genio para verlo lo ve cualquiera y por eso la etb

un campo de batalla en el que la bancada norte como suelo decir la bancada sur

están bastante enfrentadas y el enfrentamiento además irá a más mientras que el tiempo pasa mientras que gastamos un montón de dinero en una de las televisiones públicas más caras que existen y mientras que

yo por eso lo que creo es que la televisión pública lo que debe hacer es permitir que los distintos trabajadores seleccionados de acuerdo con criterios públicos

nos confirmó que el número de regulaciones que ha habido que hacer era anormalmente alto esas personas que no pasaron por un sistema de una ope

pues es una cuestión también que evidentemente hay que revisar y es una cuestión muy importante vuelvo a insistirlo que en caja o que tiene que ver con lo que es el modelo final por simplificar los términos luego en el turno de réplica

es ir más allá de lo que hace la proponente nosotros ya le digo en el tema de la etb analizando el texto que ustedes han presentado

nosotros nos vamos a abstener creemos que es necesaria una modificación de la etb pero nosotros si planteamos cuál es el modelo por lo menos la forma de designación de los altos cargos cuál es el sistema que nosotros defendemos pues mire el sistema que nosotros defendemos es un sistema

que haya una serie de candidatos que se presenten con sus currículum y con su prestigio profesional porque si hay algo que de verdad nos importa a las personas es nuestro nombre es nuestro propio prestigio profesional

y una trayectoria profesional bien que se van a cuidar y sobre todo hay transparencia en todo el proceso de adopción de decisiones bien que se van a cuidar de dejar bien clara cuál es su posición en muchos aspectos porque esa es la forma de gestionar lo público ese es el sistema de fondo anglosajón

tremendamente transparente tremendamente abierto por cierto el sistema de financiación de la etb es muy diferente del que también tenemos aquí nosotros esencialmente proponemos un concurso público para todos los

que exista un voto final porque al final tiene que intervenir entendemos también el parlamento

y ese es el sistema que yo entiendo que tiene que ser el adecuado para la selección de los altos cargos de una radio televisión pública

el fondo de la cuestión lo que está aquí y con esto ya termino mi primera intervención no lo olvidemos es

de elección de designación de los responsables del ente pero hombre detrás los que estamos en esta cámara y todo el mundo lo sabe que lo que hay detrás es una lucha de poder

que por cierto tampoco sé si se pueden quejar mucho porque el último informe que nos ha hecho llegar el director general

del grupo eh bildu me parece que el porcentaje es altísimo muy alto el más alto en relación con el resto de grupos pero en fin eso también yo creo que nos da una medida de cuál es el sesgo también de las personas que trabajan ahí que no quiere decir que las personas no tengan ideología pero a la hora de expresar noticias conducir informativos etcétera pues yo creo que

hay que informar de manera objetiva generar también opinión para eso es necesario el pluralismo y contribuir al aprendizaje

señor lehendakari hoy volvemos con la patata caliente e i te be en ocasiones los debates sobre la naturaleza de las televisiones públicas son discutibles la televisión pública vasca ha sido constantemente criticada por los distintos grupos parlamentarios por lo visto a nadie parece agradarle

otros porque quieren controlar más todavía y la minoría en este parlamento porque creemos que es partidista

al leer toda la documentación acerca del ente y su naturaleza sacamos principalmente una conclusión concreta los principios de funcionamiento de e i te be no

bildu y pnv esto es así y todos lo sabemos el debate por tanto para que deje de ser estéril por lo reiterativo del mismo parece que se puede hablar mil veces sobre e i te be

pero lo voy a centrar en el asunto de la legitimidad de una democracia cuando dos grupos tienen tal herramienta de difusión y propaganda a su servicio las teorías de la democracia algo que nos ha recordado en múltiples ocasiones félix ovejero o aurelio arteta

equilibrio en la capacidad de difusión de sus ideas hay que garantizar cierto equilibrio entre las agrupaciones políticas aunque esta idea sea a todas luces imposible de cumplir en sentido estricto

lo que nace con un objetivo concreto pluralidad informativa y política equilibrio se transforme en una pelea peligrosa cuando los políticos se ponen a gestionar en este sentido tenemos programas como los de la señora hurtado o las series de cuyo nombre no quiero acordarme donde se promociona una determinada visión del mundo frente a otras la cadena pública señores no puede ser la sexta tampoco telecinco

cuestiones que no remarquen con tanto descaro quiénes son los buenos y quiénes los malos según ustedes así por lo menos entendemos la neutralidad y así me lo explicaron a mí en la upv cuando cursé mis estudios de periodismo la realidad en conclusión es que el nacionalismo goza de ciento cincuenta millónes al año

lo vasco es bueno y todo lo demás es malo con ello han conseguido corromper nuestra democracia pues no todos jugamos con las mismas cartas

saquen sus interesadas manos de nuestra televisión porque además ustedes dicen que es nuestra que es de todos los vascos lo agradecerá etb y lo ganará además nuestra democracia

la iniciativa sobre la reforma del ente sobre el método de elección del director general

una y otra vez sobre la mesa solo se puede entender como mala praxis y un intento de controlar e i te be desde el ámbito político

la legislatura pasada y a lo largo de los años desde diversos grupos parlamentarios nunca ha habido un consenso para la reforma integral del ente

de una comisión especial para asentar las bases de la reforma de e i te be

en el siguiente intento en la legislatura número once

se volvió a aprobar la creación de una ponencia para la reforma integral del ente a partir de una propuesta de elkarrekin podemos

de la ley de creación de e i te be toca recordarlo entonces escuchamos en esta cámara que para abordar la reforma de este tipo que proponíamos se hacía necesaria una ponencia por cierto ni siquiera partió de los trabajos anteriores sino que arrancó desde cero

en los trabajos de la ponencia se recogieron numerosos y valiosos testimonios así como trabajo sociológico que venía

en aquella ocasión tal y como se aprobó en la proposición de ley en su punto número tres

sí comparecieron desde la upv para explicar la metodología el trabajo y las conclusiones que habían realizado en estas conclusiones se decía que entre las mejoras prioritarias que la radiotelevisión pública debía llevar a cabo se mencionaba

decía el trabajo se considera adecuado modificar el sistema de elección de dirección en general y del consejo de administración de e i te be

mejor representación los agentes profesionales y o dependientes de la sociedad civil

para dicho estudio el trabajo de campo realizado para dicho estudio el sistema actual de elección de e i te be por mayoría absoluta del parlamento vasco solo le parece bien o muy bien al cuarenta y uno por ciento de la población vasca si bien

uno de cada tres trabajadores de e i te be el treinta y cinco por ciento no está de acuerdo con este sistema de elección lo más llamativo de esta encuesta de este trabajo es que casi un veinticinco por ciento de los trabajadores de e i te be se negó a contestar a la pregunta sobre qué sistema de elección de dirección del ente querían

ahora que gracias a los trabajos de la universidad y el marco de la ponencia de la anterior ya tenemos identificado el problema debería ser más o menos sencillo decidir

que nos permita acometer la reforma esta reforma en un breve plazo de tiempo y quiero subrayar lo de breve plazo de tiempo a la vista de los precedentes que he mencionado anteriormente una ponencia una comisión especial dos legislaturas y un resultado tangible pues de qué sirve escuchar recoger las valoraciones de expertos y trabajadores quienes están al gobierno de e i te be no tienen la voluntad de cambiarlo a día de hoy ya se ha dado la primera de las tres mejoras prioritarias que se planteaban en el anterior documento el cambio de estructura societaria y nuestro grupo antes como ahora cree que es importante seguir avanzando en la reestructuración del ente

tanto en la de dirección del organigrama de dirección como en las tareas de control que sería el siguiente punto

hoy en día los medios de comunicación son estratégicos en muy pocos años hemos pasado de las

la influencia de los medios de comunicación en la sociedad es cada vez mayor

por ello si hace unos años el debate sobre la elección del director era importante ahora es vital

que nos garanticen de la objetividad la transparencia y la pluralidad en la dirección del grupo de comunicación y siento mucho decirlo el sistema actual de cuotas para el nombramiento del organigrama de la dirección de e i te be no puede ser considerado un medio independiente

no es un sistema justo se limita a duplicar el equilibrio parlamentario en la dirección y esto no garantiza la independencia del consejo de administración

puesto que la persona escogida por el gobierno vasco para ser director

y sin ninguna explicación ni justificación al equipo responsable

nosotros queremos un modelo organizativo más paritario y menos intervencionista queremos que al menos el cincuenta por ciento de los cargos deben ser mujeres y la elección del consejo de administración ha de ser transparente y participativa

por ello apoyaremos la iniciativa que ha traído hoy bildu a debate lo hacemos porque venimos coincidiendo en lo esencial de la misma es urgente afrontar un cambio de modelo lo era hace cuatro años
y también lo es a día de hoy muchas gracias eskerrik asko angulo jauna

consejeros señorías egun on guztioi bien a finales efectivamente de la legislatura diez

se consiguió un consenso político muy importante de todos los grupos parlamentarios acerca de la necesidad de abordar una reforma integral de nuestro servicio público

no fue sencillo y por eso creo que debemos considerarlo como un valor en sí mismo un valor señorías que a juicio del grupo socialista debe ser la base para culminar esa reforma que de forma paralela a la gran evolución

nos permita dar con un modelo de gestión que responda a los nuevos desafíos

nos permita también dar con un sistema de gobernanza que en cuanto a transparencia profesionalidad eficiencia y control responda a las exigencias del siglo veintiuno nos permita dar un modelo responda de forma óptica a los principios de pluralidad y neutralidad y un modelo que mediante la integración societaria que se ha culminado recientemente

y la formación continua de todos los trabajadores y trabajadoras de la e i te be y así todo esto consta en nuestras conclusiones que aportamos a la

para cito textualmente evitar que haya una subordinación al gobierno

de e i te be de los jefes y jefas de informativos y de redacción

el objetivo de esta propuesta que tiene forma de pnl pero que es una especie de camino

modificar lo que ya conocemos y hemos acordado que hace falta modificar y la verdad

y designación de aquellos profesionales que tienen alguna responsabilidad y la verdad es que tampoco sabemos muy bien cuál es el método de elección que nos propone porque en puridad esta iniciativa señora agirre me va a perdonar pero parece hecha como con

apatía como de relleno no sé para iniciar un periodo de sesiones no me parece que tenga entidad suficiente

sabe como yo que el procedimiento para cambiar o modificar el método no es por medio de una proposición no de ley que ni siquiera va a tener el mínimo consenso y además porque como usted bien dice para reformas importantes para las reformas estructurales para las reformas de entidad hace falta el consenso de todos los grupos parlamentarios insisto no lo digo yo eh lo dice usted en un artículo publicado

y además luego requiere modificar la ley su iniciativa hablaba de un procedimiento público sin más concreción y de procesos transparentes basados en la igualdad de oportunidades

se transparenta en esta proposición no de ley es desconfianza yo lo que deduzco

uno puede elegir confiar o desconfiar incluso como una posición vital como una posición ante la vida yo prefiero confiar pero bueno ustedes pueden desconfiar del gobierno de hecho lo hacen y desconfiar es libre

pero de todo esto lo que más me extraña es que

que es trabajadora de la casa es esa desconfianza que le lleva

que los editores y editoras y los jefes y jefas de sección

y están todos y todas o subordinados al gobierno o muy cerca de estarlo yo creo que aquí lo que toca es que podemos

y más cuando estamos hablando de profesionales de la información

que hay una editorial una línea editorial que es la que está marcada por la ley fundacional

que establece qué principios deben guiar a los profesionales a algunos les gustan más unos principios a nosotros nos gustan más todos pero los principios son los que son y son objetividad separación entre información y opinión

y el estatuto de autonomía promoción de la cultura y la lengua vasca y algunos

y el reconocimiento y respeto y atención a las víctimas y esos principios

todos nosotros conocemos esos principios no hace falta por tanto no hay ninguna necesidad de levantar sospechas acerca de si los profesionales de e i te be

esos principios por otros para actuar subordinados al gobierno esto no se puede plantear así a nuestro juicio yo creo que no se deben arrojar dudas

muy importante la mayoría de las veces sin más recompensa que muchísimo trabajo y eso usted lo conoce de manera que creo que es mucho más adecuado ir con más cuidado un poquito más de seriedad un poquito más de respeto posiblemente no sea esa su intención pero esto es así y efectivamente

cuál es el método de elección más adecuado para el equipo directivo de la e i te be pero hay que respetar las normas hay que hacerlo donde toca hay que hacerlo como corresponde hacerlo y no mediante esta pnl que me va a perdonar señora agirre con todo el respeto y yo lo aprecio

a ninguna parte también debemos defender una carrera profesional justa atractiva para los profesionales que permita sacar lo mejor de las personas que trabajan en la e i te be y no nos lo tiene que recordar porque entre otras cosas

que se aprobó por unanimidad en la que hace referencia a su iniciativa concretamente en la de dos mil diecinueve

este trabajo lo conocen porque todas estas cuestiones se han tratado y se han debatido en esa ponencia de reforma de e i te be que todo el mundo habla

en junio de dos mil dieciséis en el que el parlamento junto con otros expertos

convicción literalmente plenamente compartida de la necesidad de abordar la reforma integral

ya abogábamos por un sistema más participativo y por una carrera profesional real respecto

un director general que ha sido elegido conforme a la norma

ha sido elegido por una mayoría que es la mayoría necesaria que es la que conformamos en este caso el partido al que yo tengo el honor de representar en esta iniciativa que es el partido socialista de euskadi

habrá que ver porque de hecho ya hemos planteado unas modificaciones que generan mayores

ni tampoco les gusta que ha sido nombrado director de e i te be director de e i te be que por cierto se tiene que supeditar

pero sobre todo en su trabajo a esa línea editorial de la que le estaba hablando antes nosotros ya dijimos en esta tribuna que le otorgábamos una confianza al

ese nombramiento abrirá una nueva etapa una nueva etapa importante porque tenemos un acuerdo detrás que podemos consensuar no

de contacto y nosotros queremos que en esa etapa este señor

de tranquilidad para lograr unos objetivos que perseguimos que yo creo que son los mismos para todos una e i te be moderna adaptada a las demandas ciudadanas que recupere el carácter de servicio público que sea objetiva competitiva eficiente

atender a la realidad sociolingüística que respete el principio de igualdad

que rinda cuentas permanentemente ante la ciudadanía vasca nos parece razonable que el director general quiera conformar un equipo de su confianza usted no

usted no haría lo mismo es lo razonable para empezar a andar con un proyecto nuevo

equipo de confianza por lo menos en lo más cercano así que

momento de abrir una nueva etapa en que todos los grupos parlamentarios podamos junto con la dirección y con los propios trabajadores del ente vayamos hacia adelante y juntos para dar estabilidad a la propia e i te be y para afrontar sobre todo

muy importantes que lo decía usted y que no nos pueden descabalgar de ese futuro al que aspiramos

que sea un servicio público de calidad de vanguardia y a la orden de la ciudadanía vasca si ustedes hacen cualquier tipo de iniciativa en ese camino

consideramos que no hace falta mucho más que acudir al artículo dieciséis de la ley cinco barra mil novecientos ochenta y dos de creación

y que dice lo siguiente voy a leer textualmente corresponde al director general nombrar con criterios de profesionalidad al personal directivo del ente público y de sus sociedades notificando

al consejo de administración el sistema es claro los miembros se nombran en base a criterios de profesionalidad son nombrados por el director general

al consejo de administración quién nombra al director general este parlamento quién elige a los miembros del consejo de administración este parlamento por lo tanto no lo décimos nosotros lo dice la propia ley cuál es la base sobre la que se fundamente el sistema

y se hace además teniendo en cuenta criterios de profesionalidad

la pluralidad el acuerdo la representatividad y que además garantiza que todas las elecciones se haga en base a criterios de profesionalidad un sistema

es este parlamento parlamento que refleja la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca expresada libremente

una cámara además en la que con su actual distribución es necesario el acuerdo de más de un grupo al menos dos grupos

egonkortasuna da es importante la estabilidad para trabajar hacer equipo para avanzar colaborar para mejorar trabajar en común

como país y es que para alcanzar esas metas creemos

estar cambiando constantemente esos procedimientos de los que nos hemos dotado y que han demostrado ser efectivos no podemos estar cambiando en base a los intereses políticos de los grupos no tendría ningún sentido

todavía sería menos razonable hacerlo en base a los intereses partidistas de la minoría de todas formas los grupos de esta cámara tienen derecho de proponer los cambios que quieran faltaría más lo que nos sorprende

lo que no nos parece adecuado es el mecanismo que se ha utilizado en este caso para ello una

y es que esto pone en evidencia al grupo que la presenta y sobre todo demuestra cuál es su intención con ello generar ruido dibujar

de este país sobre e i te be y al mismo tiempo lo que consigue es faltar al respeto a un montón de personas que como he dicho antes constituyen el mayor de los activos de e i te be por un lado a una audiencia madura y con criterio propio que confía en e i te be para estar informada

una ciudadanía que apuesta por e i te be como su cadena

y por otro lado falta al respeto a esas personas trabajadoras que dan lo mejor de ellas mismas para generar contenidos de calidad y atractivos

por lo que nuestro grupo va a votar en contra de esta iniciativa evidentemente primero porque la ley ya establece un sistema justo acorde a los principios de la ley y que nosotros lo entendemos adecuado y segundo porque nos negamos a que los intereses partidistas de determinados grupos de esta cámara marquen la agenda

de poner palos en la rueda y persisten en tratar de bloquear y se mantienen en el cuanto peor mejor y lo que les duele

este grupo político y el gobierno siguen teniendo ideas para avanzar propuestas para mejorar y sobre todo y esto es lo que más les duele una mayoría para llevarlas a cabo pues sigan

se pierden en el camino nosotros vamos a seguir trabajando de la única manera que lo sabemos hacer con seriedad y con rigor sin caer en discursos efectistas

escueta creo que ha dicho nuestra pnl pero como le decía al compañero rico antes

en lo conciso y me parecen apasionantes los otros debates que usted ha planteado y me parece que como según ha anunciado

iremos debatiendo poco a poco

lo fundamental estamos completamente de acuerdo creo que nuestra propuesta va más allá de lo que ustedes proponen pero bueno

a la señora gallástegui también le recuerdo decía usted que

con el consenso de esta cámara pero también le digo que también ha sido el director que más votos en contra ha tenido en toda la historia de e i te be

si cumplieran los acuerdos tomados en esta cámara que son los que citamos en nuestra pnl es cierto que

pero no se cumple y esa es una de las razones por las que hoy se debate esta

a ninguna parte pnvko ordezkariari

bien pues en el último turno este de intervención ya estamos se nota cerca de la hora de la comida le han dejado solo al lehendakari al lehendakari su gobierno le ha dejado solo

que hombre yo creo que es de gran interés al contrario de lo que se decía yo hoy parece que es el día en el que los grupos que sustentan al gobierno que es el gobierno en sí mismo le haga oposición a la oposición oiga es que esta enmienda que ustedes o esta pnl es una pérdida de tiempo es que esta enmienda o esta

está para la labor de control del gobierno y yo por eso creo que la iniciativa que se ha presentado que podría ser efectivamente

pero vamos yo creo que esta iniciativa porque nos ayuda a todos a ir fijando las posiciones

se ha dicho también que hombre que la legislación tiene que tener estabilidad y tal hombre es que

ochenta y dos en los mundiales no en españa y la última reforma que precisamente es la de la

jo yo era muy jovencito en aquella época el señor díez también yo creo que sería jovencito en aquella época yo creo que desde entonces hasta ahora

una reflexión sobre qué tipo de radiotelevisión queremos yo simplemente voy a sintetizar mi intervención y lo que nosotros proponemos es una radiotelevisión pública que se rija por los criterios de transparencia de mérito de capacidad de profesionalización profesionalidad en todo caso siempre tanto en los trabajadores como en los directivos porque eso es lo que les dota de independencia

no queremos políticos porque tal vez si la etb tuviera un director general y un consejo de administración elegido por criterios profesionales y no políticos nos habríamos ahorrado estos últimos meses emisiones que nos avergüenzan a muchos vascos por ejemplo recuerdo

el consejero de cultura criticaron la emisión del programa euskal herria y libertad

tal vez si la etb tuviera un director general y un consejo elegidos por criterios profesionales y no políticos no tendríamos que soportar que la guardia civil fuera retratada como golpista corrupta torturadora en prime time tal vez si tuviéramos un director general y un consejo elegido por criterios profesionales y no políticos

de las instituciones del estado presentando a españa como una democracia bananera

las fuerzas de cuerpos de seguridad del estado o los partidos políticos

critica a los partidos políticos de mayor implantación sobre todo aquí

tal vez si la etb tuviera un director general y un consejo elegidos por criterios profesionales y no políticos

que ya exigimos que se retirara y que da la vuelta por completo a los hechos sucedidos en alsasua donde se convierte a los agresores en víctimas y se empatiza

en fin en síntesis yo creo que en el fondo de la cuestión lo que aquí subyace como dicen los americanos el elefante en la habitación hay una guerra

entre dos tendencias nacionalistas y esto es una cosa evidente hay una guerra por el control de la etb

eso hay que reconocerlo y nosotros frente a esto lo que proponemos es un modelo basado

en la independencia de criterio y sobre todo en la eliminación del sectarismo político porque es que no hay que olvidarlo es que la etb no es del gobierno la etb no es de la oposición es que la etb la pagamos

por eso nuestra posición es esa hemos anunciado que nos abstendremos en la propuesta yo no la voy a criticar tanto en esos términos pero sí nos abstendremos y luego votaremos a favor de la nuestra que entiendo que si la suya

que una y otra vez estamos aquí debatiendo habrá que seguir trayendo este debate a la cámara y decían que ya se habían puesto

elkarrekin podemos sí trajo proposición de ley y fue rechazada sobre los cambios de la dirección de etb y en la reforma de la etb y fue rechazada o sea

rechazadas por lo demás muchas gracias eskerrik asko

sí gracias presidenta muy brevemente bueno coincido con usted en la última

de trabajar todos juntos eh eso también para conseguir la

pero yo creo que también es importante lo que le he comentado antes acerca de la necesidad de dar estabilidad a la dirección que acaba de tomar posesión de su cargo que les recuerdo que lo fue

dos meses aproximadamente dos o tres meses yo creo que a finales de octubre yo creo que

grupos parlamentarios creemos que hace falta una redefinición más amplia también y actualizada de lo que es la misión del propio servicio público

la atención a la infancia y a la adolescencia que incluya el compromiso

ahí vamos a coincidir también vamos a coincidir en un diseño de gobernanza más profesional más eficiente y menos politizada

que la politización es lo que existe en aquellos lugares donde ustedes no tienen el control de estas instituciones y no es lo mismo eso que el control político de algunas instituciones y organismos que todos sabemos que es necesario pero bueno de eso ya hablaremos en otro momento y también tenemos

de hablar y de redactar y de incidir en cómo queremos que sea el nuevo contrato programa que debe ser ese compromiso aprobado por el parlamento

a la duración de una legislatura para contribuir a la planificación

yo creo que ustedes y nosotros y el resto de grupos parlamentarios de este foro podemos coincidir

de dar estabilidad y de querer como decía una e i te be no solo como la queremos sino también como la merecemos al servicio de la ciudadanía vasca y garantizando todos esos principios que no están pasados de moda sino que tienen que

insisto que si vienen a este parlamento iniciativas que tengan calado no este tipo de iniciativas que en fin

en el que yo creo que incluso todos podemos coincidir no en el texto real en el texto presentado sino en la idea de hacer una e i te be más participativa

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor angulo dice usted que
tienen toda la legitimidad de traer esta propuesta nadie lo ha negado de hecho lo hemos reconocido en nuestro propio discurso es tan legítimo presentar los cambios que se quieran como

razonándolo argumentando debatiendo es la misma legitimidad la que tienen unos y la que tenemos otros y otras

usted nos ha dado pues un argumento que no quieren estar

sesgado yo tengo otro argumento y ese argumento es que todos sabemos lo que pasa en este país todos sabemos

se les señala se le estigmatiza se le acusa de ser unas cosas que realmente no son y eso además se ve profundizado

al que se someten las instituciones las instituciones públicas e i te be varias instituciones por lo tanto si siguen en ese camino de desprestigiar e i te be

porque después cuando vuelva a la redacción tendrán el estigma de haber sido

del poder ya le he dicho en mi primer turno el sistema garantiza la pluralidad porque este parlamento es la base de ese sistema y este parlamento es plural otra cosa es como ya le han dicho que esa pluralidad a usted no le guste es legítimo que no le guste o que directamente lo que no le guste sea eso la pluralidad

de todas formas si este sistema no les gusta usted ya lo ha dicho el día que tengan la posibilidad y la responsabilidad de gobernar tendrán la oportunidad de cambiarlo y yo les escucho y digo va a ser pronto porque

todo mal pero echo la vista atrás y digo hace seis meses

hace dos años antes de las elecciones municipales y forales ustedes ya decían que el pnv lo hacía todo mal hace quince

pero qué ha ocurrido desde entonces que el pnv ha seguido ganando las elecciones y quien ha tenido que cambiar constantemente una y otra vez la estrategia ha sido siempre la izquierda

o sea que la gente vive en este país que la gente nos conoce a nosotros pero que también os conoce a vosotros y que la gente sabe cómo actuáis que la gente sabe

en todo lo que ha podido en este país en las asociaciones de vecinos

todo por lo tanto oye lecciones ninguna eh besterik gabe eskerrik asko

en primer lugar en la iniciativa que traemos hoy al parlamento vasco consideramos necesario

en la comunidad autónoma del país vasco y si fuese necesario que así lo estima el grupo popular reorganizar los recursos actualmente existentes y la posibilidad

por otra parte creemos que en el territorio histórico alavés es ya necesario incrementar la dotación de nuevos recursos de soporte vital avanzado con médico

en álava actualmente existen dos soportes vitales avanzados con médico para todo el territorio

en llodio sin embargo se ha constatado que estos dispositivos son insuficientes teniendo en cuenta la población y la extensión de nuestro territorio a veces es necesario en álava como decía existen dos ambulancias medicalizadas

pero la de llodio también todos sabemos que por su proximidad al territorio histórico de bizkaia mayoritariamente realiza su actividad

queda por tanto una ambulancia medicalizada en vitoria para el territorio de álava

que a veces está ocupada por desplazamientos interhospitalarios no solo entre los hospitales de vitoria sino entre hospitales de los distintos territorios nos quedamos

disponibilidad de un recurso de estas características las propias recomendaciones de la oms como

sabemos sobre el ratio de población recursos de ambulancias marcan como mínimo una unidad de estas características por cada cien mil habitantes y la ambulancia de mondragón como ustedes también

tampoco viene a vitoria uno de los argumentos que seguramente

al gobierno especialmente el partido nacionalista vasco será que la red de ambulancias el servicio de ambulancias y transporte sanitario urgente trabaja en red

alavés algunas veces ha venido pero sí que es cierto que raramente viene a vitoria la realidad es que la falta de

ocasionando claramente problemas y que no se puede mandar una uvi móvil porque la que realmente está operativa a veces

una única unidad en este sentido numerosos avisos que deberían

conllevan que se movilice como decía un recurso de estas características voy a poner algunos ejemplos recientes algunos

que trabajan en este ámbito nos los han dado a conocer y por lo tanto por lo menos yo creo que los portavoces que llevamos esta materia somos conocedores de este asunto y de la carencia y el déficit que hay en esta materia concreta el otro día nos han trasladado que por

también hay traslados de txagorritxu a santiago de pacientes que deberían ir o ser trasladados en una uvi móvil y no lo pueden hacer porque está ocupada

que como a nadie se le escapa por ejemplo un accidente en el que puede haber varias personas involucradas de una gravedad que precise la atención

si se manda una porque solo hay una en ese momento

pacientes se le pone la uvi

en consecuencia bueno creemos que llevamos con esta carencia

abordarla y que debe de ser una prioridad para este gobierno como decía nosotros así lo hemos entendido en los presupuestos y en ese sentido los hemos enmendado introduciendo enmiendas específicas para el incremento de este tipo de recursos especialmente en el territorio histórico de álava sin perjuicio de que también en todos en el resto de territorios

también incrementar estos dispositivos no solo con médicos sino cualquier otro tipo de soporte sé que hay una enmienda de transacción suscrita entre

de acuerdo en el último punto pero sí que vamos a apoyar los dos primeros puntos si nos permiten la votación por puntos el primer punto

y ubicación de los soportes vitales avanzados con el fin de responder a las eventuales emergencias que se puedan producir en la comunidad autónoma del país vasco y

los recursos creemos que va en consonancia con nuestro primer punto que hablaba

y en su caso de incrementar los recursos si fuese necesario y por lo tanto bueno pues creemos que va en línea con la propuesta que proponíamos en nuestro primer punto y el segundo de ellos hace referencia a la carencia existente en este momento en álava

medicalizados para dar respuesta a las necesidades existentes por lo tanto apoyaremos estos dos puntos de la enmienda de transacción

bien nosotros compartimos la preocupación de la señora garrido porque efectivamente

existen carencias en cuanto a los recursos existentes para hacer frente a las necesidades asistenciales de urgencias y en concreto en cuanto a recursos materiales y humanos relacionado con las ambulancias medicalizadas y compartimos también

hay una carencia concreta específica con la existencia de tan solo dos unidades de soporte vital avanzado con médico

en el tiempo como una cantidad insuficiente para la población y las características del territorio de araba

necesita cuando menos contar con al menos otro soporte vital avanzado con médico es algo además que trabajadores y sindicatos han venido reclamando

en más de una ocasión al gobierno vasco sin éxito desde luego hasta la fecha esta carencia ha tenido consecuencias en ocasiones

que han estado de relieve incluso en los medios de comunicación y que lógicamente

que es consciente de los problemas que existen y de las implicaciones que conlleva y puede conllevar la insuficiente dotación de recursos en una cosa tan delicada como las emergencias ahora bien para elkarrekin podemos izquierda unida el problema no se circunscribe solo a la necesidad de un aumento de ambulancias ni en araba

el problema pensamos que es general en emergencias ni siquiera se circunscribe tampoco exclusivamente a la red de transporte

nosotros pensamos que el modelo público de emergencias de euskadi dista mucho de ser un buen modelo y que arrastra problemas serios tanto en la red de transporte sanitario como en los centros de coordinación ambas patas del sistema además

un innecesario grado de privatización que ha generado multitud de problemas para el funcionamiento del servicio para los profesionales de emergencias y para las personas

incluíamos y era la base de nuestra enmienda la cuestión del modelo público o publificado que entiendo que el partido popular

de una posible transacción no estamos hablando además de problemas que surjan con la pandemia como de alguna manera

que se deduce un poco de la enmienda de los grupos que sostienen al gobierno obviamente nuestro grupo no va a negar que la pandemia ha complicado aún más la situación y ha aumentado las necesidades asistenciales para emergencias

recursos pero los problemas son anteriores y los llevan planteando los propios profesionales de emergencias desde hace años problemas que como decía no se reducen

son los encargados de recibir las llamadas de urgencia y emergencia sanitaria en estos centros trabaja personal médico de enfermería auxiliares administrativos operativos veinticuatro horas al día en dichos centros se vienen arrastrando desde hace muchísimos años situaciones de precariedad laboral que afectan a un trabajo que es

para nuestra sociedad existiendo un déficit importante en el dimensionamiento del personal en todas las categorías el personal viene denunciando una situación que ellos han calificado también de desborde en muchas ocasiones

ha denunciado una gran penosidad laboral por la saturación y excesiva demanda de llamadas llamadas que en ocasiones se acaban bloqueando o se pierden lo cual obviamente puede suponer un riesgo para la seguridad de las personas que necesitan asistencia se vienen denunciando turnos en los que hay menos médicos de lo establecido realizando atención durante doce trece horas seguidas de forma interrumpida de día

o teniendo que realizar de forma urgente una valoración para decidir en unos minutos cómo resolver situaciones en las que puede estar en juego la vida de personas todo ello optimizando recursos porque efectivamente

el personal sustituto de médicos y médicas se ve sometido a unos ritmos de trabajos irregulares

muchas veces se les avisa para acudir a trabajar sin la suficiente antelación para organizar su vida personal y familiar o por ejemplo como denuncian también los sindicatos no se negocian los calendarios de trabajo con las plantillas lo cual

en ocasiones a un exceso de horas laborales a la plantilla todo esto repercute negativamente en una asistencia de primer orden

un servicio que es crítico en muchas ocasiones inspección de trabajo instó hace dos meses al director gerente de emergencias

realizado por lo que se ve hace seis años y que no había sido ejecutado en seis años por los responsables un requerimiento fruto de una denuncia realizada en este caso por el sindicato esk en relación a la regulación de los tiempos de descanso para evitar la fatiga y mejorar la atención de los profesionales

cualquier cosa y se debería tomar en serio cosa que no se hace cuando inspección te tiene que llamar la atención ante un requerimiento por no cumplir un requerimiento

hace seis años por lo tanto en los centros de coordinación en ocasiones tenemos una plantilla que denuncia estar exhausta física y mentalmente que se ve sometida a cargas de trabajo

lo cual repercute en una mala asistencia a la ciudadanía lo que en un servicio como este

en riesgo las vidas el modelo de gestión vía subcontratación de empresas privadas en nuestra opinión está también detrás de los problemas que tiene

ni en ambulancias ni en este caso tampoco en un centro público de coordinación de emergencias

no pintan nada a las empresas privadas más allá de su intención de obtener unos réditos económicos a costa o bien de un peor servicio o bien de las condiciones laborales o como pasa en este caso bien

las trabajadoras del servicio telefónico de atención de urgencias están además incomprensiblemente adscritas a un convenio de telemarketing aunque ahora ha cambiado el nombre del convenio pero es el convenio de telemarketing lo cual

ni pies ni cabeza para un servicio con unas características tan especiales y críticas como son las emergencias ahora están pendientes del próximo pliego

buena medida sus condiciones de trabajo pero es que nosotros pensamos que además de sus condiciones de trabajo depende de esas condiciones de trabajo

que es fundamental y crítico nosotros por eso pensamos que no se trata solo de aumentar

pero pensamos que hay un problema más de fondo con las emergencias en euskadi pensamos que hay un modelo nefasto cuando hablamos de un servicio de primer orden que tiene un grado de concertación privada elevado que pensamos que se debe desechar y que está generando serios

del transporte sanitario lo hemos expresado en más de una ocasión el sector privado de las ambulancias vive a costa del dinero público de manera casi casi exclusiva

de un servicio como es la sanidad pública porque además muchas de estas empresas no tienen una buena praxis han tenido

pero también en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y en el trato con la administración pública con el departamento con el propio gobierno vasco

alguna de estas empresas le ha dejado tirado en el último momento por lo tanto para nosotros desde luego era importante hablar de la publificación de este modelo

en este caso a la señora garrido proponente de esta iniciativa que en caso de que hubiera una posibilidad

aprobase una iniciativa para dotar de esos recursos en este caso hacen falta en araba nosotros nos podemos dejar por veinticuatro horas

pelos en la gatera pero bueno parece ser que tampoco por parte de los grupos que sostienen al gobierno disposición ni tan siquiera a hablar de eso y por lo tanto nosotros hemos firmado esa enmienda en este caso con
la señora ubera con el grupo eh bildu estamos de acuerdo en una cuestión muy sencilla amaitu mesedez

recursos sí pero el modelo es muy diferente pensamos que ustedes en realidad están

gobernando aquí nos parece mucho más importante la cuestión de modelo

ha dicho que hubiera estado dispuesto a una negociación quitando el último punto de la transaccional y ha dicho que es que los grupos del gobierno no estábamos dispuestos

en este pleno sobre una posible transaccional en este punto no ha habido comunicación ninguna con este grupo

no no no ha habido ninguna comunicación con este grupo y ahora

nos ha planteado el partido popular se registró el veinte de noviembre

juntas generales de álava una iniciativa bastante similar también por el grupo popular y ahí se dio

al ver que los argumentos que se están empleando

que sea así en este sentido yo quiero abordar este debate al igual que mis compañeros y mis compañeras

generales de álava del grupo socialista evitando la bronca y sobre todo huyendo de determinados discursos dirigidos a dibujar un falso escenario de abandono institucional

he creído que eso sea razonable y tampoco lo creo para este debate nosotros nos acercamos a este debate con una actitud constructiva alejada de victimismos y de discursos partidistas porque partimos de una premisa

se acerca mucho más a la realidad y es que a todos los que estamos aquí representados a todos los grupos parlamentarios sin excepción

que vizcaínos que alaveses que guipuzcoanos dispongan de los medios sanitarios más adecuados para ser atendidos como este debate ha sido recurrente

en los ámbitos de álava es fácil acceder a los datos referidos a los recursos de los que se disponen en esta provincia en la red del transporte sanitario y

debates me voy a centrar en que existe un planteamiento concreto

de álava hecho por el partido popular y yo sí quiero analizar que

enmiendas que aquí se han registrado pues no se baja tanto al detalle como se ha bajado

en las juntas de álava donde cada grupo ha ido proponiendo un número concreto de ambulancias es verdad que en la transaccional y en la iniciativa sí se ha dado un número concreto de ambulancias en eso coinciden pero bueno

ubicadas pero yo creo que sí hacemos un ejercicio de honestidad lo lógico es que tal y como planteamos en nuestra enmienda el gobierno vasco evalúe

se requiere alguna modificación tanto en las dotaciones actuales como en los protocolos de coordinación entre estos recursos y el conjunto de la red de asistencia sanitaria de euskadi yo creo que es una enmienda coherente con la necesidad de conocer la demanda habitual de los servicios sanitarios de urgencia y su nivel de prestación y especialización

que estas decisiones no pueden ser fruto de un mero debate parlamentario o de un juego de mayorías o minorías sino que tiene que responder

nada más y muchas gracias eskerrik asko rico jauna

el grupo popular ciudadanos nos trae un debate sobre la red de transporte sanitario de urgencia de osakidetza

de dos nuevos recursos de soporte vital avanzado con médico y que tengan base en araba es decir dos ambulancias medicalizadas más con base en araba

y todos conocemos su contenido y además catorce catorce horas ahora son las quince siete hemos conocido la

elkarrekin podemos de la que no habíamos tenido ninguna información

participación ustedes vienen con un mensaje alarmista que no se corresponde para nada con la realidad

asistencial de araba quieren hacer ver que todo va mal alegan abandono institucional y agravio comparativo hacia araba respecto al resto de territorios y

o se ponen dos ambulancias más de un tipo concreto de estas medicalizadas

pero la realidad no es esa la realidad es que debido a la buena gestión

del gobierno vasco de osakidetza y de emergentziak osakidetza durante años y a su mejora continua la red asistencial es una

una asistencia sanitaria que garantiza que está garantizada para toda la ciudadanía allí donde se encuentre en cualquier parte del territorio ustedes

no quieren oír ni saber nada más como hemos visto y pero no quieren ver que para hacer un correcto análisis evidentemente hay que ver el sistema en su totalidad y dicen

evidentemente vamos a argumentar que se trabaja en red porque es que si no no hay forma de analizar su petición concreta y es que es tan importante saber que se trabaja en red

porque no se puede atender no se puede atender a cuestiones aisladas

los recursos en su totalidad la respuesta a cualquier urgencia de emergencia se realiza teniendo en cuenta a todos ellos su capacidad asistencial individual como actuaciones en equipo

no hay muros entre zonas entre territorios los coordinadores distribuyen los recursos por todo el territorio según la demanda y necesidades

para cubrir otra trabajar en red significa no tener

por todo el territorio y acudir allí donde se necesite y en el menor tiempo posible así la estrategia de respuesta asistencial en araba está adaptada a su singular

y para el valle de ayala por su población y confluencia de riesgos como ejes viarios aeropuerto núcleos industriales etcétera y en estos en valle de ayala y gasteiz se concentran el mayor número recursos asistenciales misma estrategia que se sirve

por otro lado para las zonas rurales de araba se estableció otra estrategia que es similar a la de otras comunidades autónomas y que se basa en una coordinación integración funcional entre los dispositivos de atención primaria

es posible que siempre no se haya llegado a tiempo y ustedes han dado unos ejemplos nosotros lamentamos siempre sinceramente cualquier hecho desgraciado que ocurra

se hubiera podido evitar pero lo que no nos parece responsable es crear alarma en relación a este asunto y hacer

además no se trata de más y más no se trata solo de cantidad se trata de una buena coordinación de una gestión adecuada y eficaz

que estamos hablando de recursos públicos en cualquier caso osakidetza cuando ha entendido que era necesario ha hecho las modificaciones oportunas y esto lo hemos visto y esto lo hemos visto siempre y especialmente para hacer frente a la pandemia del covid

como no nos cerramos entendemos oportuno poder pedir al gobierno vasco

que haga una evaluación para analizar cuál es la situación tanto en lo relativo para hacer frente al covid como en la demanda habitual de la red de transporte urgente y si es necesario

oportunas pero que como digo se han ido haciendo continuamente de hecho desde que se inició la pandemia

en cinco ambulancias de diferente tipo tres de ellas con capacidad de ser medicalizadas que atienden exclusivamente a pacientes covid por lo tanto

con sus parámetros y luego por otro lado tenemos un real decreto estatal del año

en españa que determina las características de los soportes vitales avanzados es decir o

en la que no siempre cuando habla de las dotaciones que tienen que tener no siempre exige médico dice y tendrán médico solo cuando la asistencia a prestar lo requiera por lo tanto siguiendo eso osakidetza

se hace una norma que se prevén diferentes tipos de recurso bien hecho probablemente

con el conjunto de recursos y así siguiendo esta recomendación de esta o sea la recomendación no las determinaciones de este real decreto

soportes vitales avanzados con enfermería situados en gasteiz y amurrio

en gasteiz y laudio trece ambulancias de soporte vital básico cinco recursos específicos para covid de estas que hemos dicho que son de diferente tipo para adaptarse

en total de los diferentes tipos eso solo con base en araba y además se comparten otros recursos que se trabaja con ellos de forma coordinada el que se ha dicho la ambulancia medicalizada con base en arrasate que evidentemente es compartida con gipuzkoa y un helicóptero el helicóptero medicalizado de osakidetza que evidentemente lo compartimos en todo euskadi pero que es un recurso que también atiende araba

acuerdos con otras comunidades autónomas en lo referente a zonas limítrofes de araba

en concreto con la rioja y castilla león recursos con base en haro logroño miranda de ebro y ustedes insisten en que la de llodio

núcleo la segunda comarca con más población de araba y que en su recorrido atienda también a bizkaia pues hombre la geografía vasca es la que es a veces tozuda

la organización sanitaria ha determinado como ayalesa se lo digo que

nuestro hospital de referencia sea galdakao y evidentemente galdakao es bizkaia y por el recorrido también hay núcleos de bizkaia

no creo que sea pecado no estamos compartiendo y

entendemos que su petición es parcial y que habría que ver el conjunto lo que nos preocupa es que quieran generar alarma con esta cuestión y

y que osakidetza seguirá adaptándose según las necesidades y circunstancias eta horregatik

pero usted sabe que el ochenta por ciento de la población de álava está en vitoria y yo ya entiendo que usted es ayalesa y que sí efectivamente en la zona pues está llodio está amurrio y que tiene una población importante y serán

más poblados después de vitoria pero es que en álava el ochenta por ciento de la población está en vitoria

se trata de dar respuesta allá donde hay un problema y aquí está el problema ya perfectamente detectado

son ocasiones puntuales porque luego usted también conoce la realidad del territorio alavés y sabe perfectamente porque lo conoce porque además es

para hacer un traslado al hospital porque hay muchas veces que se llama a la ambulancia y que se ve que no llega

de las ambulancias medicalizadas pero es que mire señora larrauri si vamos al número de ambulancias claro en álava tenemos dos pero es que la de llodio el ochenta por ciento de su actividad la desarrolla en bizkaia es más

la gestión del propio servicio y la movilización de este recurso se hace precisamente desde bizkaia en bizkaia tenemos cuatro más la de llodio cinco y además usted si repasa el mapa de

en álava y en bizkaia a la vez porque se entiende claro está ubicado en álava se gestiona desde bizkaia y presta servicio en bizkaia y en gipuzkoa son cinco ambulancias

cuando efectivamente hay distintos recursos para realizar un transporte sanitario urgente efectivamente

pero no un médico sino porque este tipo de recursos lleva también unos dispositivos especiales que son los que utilizan los médicos en situaciones también especialmente problemáticas en los que estamos hablando de salvar o no salvar una vida estamos hablando de momentos absolutamente trascendentales en la vida de una persona

también supone que el ingreso sea de una determinada forma o pueda ser de una determinada forma o de otra por no lamentar

por lo tanto creemos que ese gasto adicional que en este momento podría suponer un gasto al gobierno luego además redundaría en ahorros porque precisamente también a la hora del ingreso hospitalario la persona en concreto podría incluso llegar

con una mejor atención no se trata de agravios comparativos esta parlamentaria está

y cuando ha habido deficiencias en otros territorios respecto al territorio alavés se han planteado y no ha habido ningún problema claro ustedes me hablan del estudio pero es que llevamos con el estudio pendiente desde hace mucho tiempo es que ya son legislaturas las que estamos pidiendo el estudio yo es que creo que no quieren hacer el estudio

porque al final ese estudio va a dejar claramente de manifiesto la situación de carencia y de déficit que hay en el territorio alavés respecto a las ambulancias medicalizadas y que tenemos dos

trabajamos en red pero esa red en muchas ocasiones no es suficiente

y encima cuando está la ambulancia medicalizada ocupa en realizar transportes interhospitalarios aquí y

en este tema y los profesionales que trabajan en este ámbito es que ya son muchas ocasiones en las que vitoria se queda toda una mañana

está ocupada en un traslado por ejemplo como ha pasado recientemente a galdácano al hospital de basurto y nos quedamos sin uvi móvil y vale puede venir la de mondragón si viene

yo creo que está absolutamente justificado la necesidad de este recurso y mire si vamos al número de habitantes

quiero decir que la realidad de los datos también habla por sí misma y para finalizar simplemente decir que

pero este grupo a la hora de presentar esta iniciativa lo que ha pretendido es precisamente centrarse en donde hay un problema creemos que ahora hay una carencia en relación a los recursos

que es hora de resolverlos sin perjuicio de que obviamente se realice

de la enmienda de transacción suscrita entre el grupo podemos

bien ya me ha quedado claro que me han echado de menos esta semana
que no les he llamado para negociar

de la señora garrido ella sí se ha puesto en contacto conmigo y yo he empezado a hablar de contenidos con ella y con la señora ubera que también se puso en contacto conmigo la próxima vez prometo que les voy a llamar aunque sepa que hay muy poco recorrido para llegar a un acuerdo porque

uno básicamente para que se analice de otra forma a la que ustedes lo plantean porque es lo que ya plantean en su enmienda otro para dotar de más recursos concretos en este caso en araba y un tercero sobre la cuestión de la publificación del modelo

que no se iba a aceptar por los grupos que sostienen al gobierno la publificación pue desde luego estoy totalmente seguro que no iban a negociar conmigo eso a raíz esta proposición no de ley

demasiado no íbamos a llegar a ningún sitio por mucho

llamarles la próxima vez es verdad que no se trata de generar

los problemas que se han visto en concreto en araba los conocemos todos por los medios de comunicación y no creo que vayamos a acusar este parlamento pues a los medios de comunicación de pretender generar alarmismo

cuando han pasado cosas o cuando se han visto las carencias que han tenido afecciones y porque además también llevamos escuchando a los profesionales los profesionales a las trabajadoras y trabajadores desde hace mucho tiempo pues señalando este tipo de cosas no solo

en araba sino sobre el conjunto del modelo y por eso para nosotros señora garrido era muy importante

del conjunto del modelo porque sí se trabaja en red a nosotros nos parece bien que se trabaje en red definiendo a ver lo que es trabajar en red el problema no es que se trabaje en red el problema es que

de cosas públicas privadas que al final está generando un mal modelo y un modelo

que tiene pues afecciones a la ciudadanía tanto

en la pata de los centros de coordinación en los centros de coordinación también pues el hecho de que trabajen trabajadoras de empresas privadas para nosotros no tiene ningún sentido o sea quien está en la centralita recogiendo las llamadas de emergencias a nosotros nos parece que es una cuestión tan fundamental que y se debería cuestionar que esto tiene que ser un servicio público gestionado

de manera muy directa pienso lo mismo para las ambulancias porque me parece un servicio sanitario

hablar de esta cuestión y si hubiera capacidad de haber llegado a acuerdos como decía

nosotros lo podemos dejar a un lado en una iniciativa concreta que se vaya a firmar

esta yo sé que los grupos que sostienen al gobierno no van a negociarla la cuestión de dotar de más recursos en concreto en araba ya sabíamos que tampoco y se ha visto

un debate viejo pues bueno bien si nosotros podemos abstenernos perfectamente a la enmienda que han presentado ustedes que analicen cómo está el modelo pues no hace daño a nadie desde luego en cualquier caso

kutsatzen da se acabó se acabó

tenía pensado no hacer una segunda intervención pero le estoy cogiendo gusto a esto de las réplicas la verdad es que

a ver preocupación ninguna señor hernández ninguna

como hablamos con otros grupos de esta cámara yo simplemente he aclarado porque usted ha dicho que no se había

los partidos que sostenemos al gobierno no habíamos entrado o sea no habíamos accedido a eso entonces

que a nosotros nadie nos ha trasladado ninguna propuesta transaccional si no

me hubiera dado igual cada uno tiene que saber qué es lo que hace con sus iniciativas pero claro nos ponemos muy estupendos con el

pero a veces las matemáticas básicas no se nos dan muy bien si ustedes quieren

matemáticamente tienen que contar con nosotros es muy simple es muy llano por lo tanto

lo lógico es que se plantee hablar con los grupos que pueden permitir llegar a un acuerdo sobre esa iniciativa porque dan la mayoría

es que igual hay alguien que no está buscando sacar adelante un acuerdo igual lo que está buscando es traer aquí un debate y si incluso no tiene un acuerdo

mejor podemos entrar a debatir muchas cuestiones se ha dado por la portavoz del grupo nacionalista los datos y podríamos entrar a debatir eso es suficiente eso no es suficiente bueno nuestra enmienda es más clara aquí quien está diciendo que hay un problema

en base a dos parámetros la incidencia del covid y los usos de esas ambulancias yo no le veo demasiada problemática a la enmienda que proponemos de hecho

la lógica no entiendo dónde está el problema

igual como dice el señor gordillo lo de la oposición de la oposición

analizo lo que plantea la oposición por cierto

el voto a favor en algunos puntos en el anterior punto que hemos tenido que se me ha olvidado y me parecía bastante descortés así que se lo hago también desde este atril pero claro a mí hay una cosa que me llama la atención en esa enmienda transaccional que ha firmado

todos estos grupos apoyaran su iniciativa y aquí no haya sido así apoyar a la iniciativa del partido popular

que aquí más que llegar a un acuerdo hay quienes intentan plantear

pero bueno me voy a la enmienda transaccional y lo que me ha llamado la atención

reorganizar los recursos actualmente existentes punto segundo resolver la carencia existente perdón en qué quedamos

o ya hay una carencia porque si ya hay una carencia para qué hacemos el estudio

me ratifico en la enmienda que hemos planteado el grupo socialista y el grupo nacionalistas vascos

los datos están ahí todos sabemos cuáles son la dotación de ambulancias de servicio vital avanzado que tiene álava se ha planteado que puede existir un problema

y la dotación la afección que ha tenido con el ámbito del covid y en base a eso que se tomen las decisiones
yo creo que es simple creo que es lo acertado y creo que es lo lógico nada más y muchas gracias eskerrik asko rico jauna euzko abertzaleak

no interesaba esa foto ese titular o no sé qué no interesaba pero no o no oírnos

y no ha habido ningún interés elkarrekin podemos y luego ha sido transado con bildu insiste en los diferentes tipos de contratación de los recursos en el modelo de contratación yo creo que este no es el debate yo creo que en este momento a la ciudadanía no es

tienen que estar garantizados respetamos las aspiraciones legítimas de todo el grupo de trabajador pero yo creo que en este momento y en el debate que ha traído la señora garrido

lo que aquí estamos hablando es si el servicio si la red de transporte urgente en araba

de osakidetza es correcta y lo que entendemos es que es correcta y desde luego cuando se llama a una ambulancia yo creo que

está garantizado entonces no entendemos

qué es el debate habla la señora garrido de los ratios de la oms

la oms no está hablando en este momento de ningún ratio población ambulancia no creo me ha sido imposible dar con ellos si los puede aportar se lo agradezco pero yo creo que eso no es la oms no está hablando de eso y desde luego osakidetza desde luego respeta todos los parámetros

en el derecho comparado en diferentes países los

estados unidos están ahora utilizando sistemas muy diversos en los que principalmente van con personal técnico y no con médicos solo el médico se suba a la ambulancia en situaciones muy extrañas con lo cual

a un estudio no no nosotros no hemos traído aquí este debate nosotros entendemos

la asistencia de emergentziak y de osakidetza es adecuada y además estamos diciendo que osakidetza si entiende que haya unas necesidades

los recursos de personal y de ambulancias en concreto en cinco o sea se va adaptando

hemos considerado adecuado solicitar una evaluación de nuevo porque como les décimos esas evaluaciones se están continuamente realizando dice la señora garrido que araba se queda desprotegida y que

creo que hay que ir más allá de esos límites territoriales yo creo que en este momento de la historia de la vida esos límites esas rayas entre territorios deberían también estar superadas y ver un poquito ver un poco más allá y desde luego

se utiliza la misma estrategia que otras comunidades por ejemplo la de castilla león o la de andalucía que gobierna el partido popular con lo cual no diga

estrategia y además están dotados hay recursos y los recursos se utilizan a veces estarán ocupados pero es que hay otros y se utilizan según demanda

y hay cobertura y la de araba la de llodio con los dos puertos a bizkaia no el ochenta por ciento no son pero desde luego son donde hay demanda esa ambulancia va donde hay demanda y no son el ochenta por ciento

insistimos en la red y el agravio comparativo a araba ha quedado claro que no araba decía alguien que

y sin más escuchamos nosotros escuchamos también a los trabajadores pero a todos no solo a un grupo escuchamos a todos y yo creo que la ciudadanía ha entendido perfectamente cuál es nuestra labor y aquí